por tanto las modificaciones introducidas hacen referencia a actualización y agilización del procedimiento de modificación del catálogo del plan de carreteras la modificación de la jerarquización de la red la adaptación de ese procedimiento teniendo en cuenta

en ámbito territorial medioambiental y de transporte y la modificación del régimen para la revisión de la red la red objeto del plan

y se trata al conjunto de carreteras que atendiendo a la importancia de los tráficos enlazan los territorios históricos entre sí o con carreteras de las comunidades autónomas limítrofes

y casi la totalidad de la red básica en cuanto a la modificación de la jerarquización de la red se han cambiado los principios generales de denominación de la red de carreteras

legislación vigente y la otra novedad es que se añade un nuevo concepto una nueva jerarquización que es la denominada red complementaria y es la que conecta los itinerarios de alta capacidad con las arterias urbanas en tercer lugar la adaptación del procedimiento de elaboración del plan bueno lo que pretendemos es

nueva que se ha introducido desde el ámbito territorial desde el ámbito ambiental y de transporte y que se incluya dentro de esta ley que modifica los planes de carreteras y además

introducirse de una forma bien tasada en el artículo siete de la misma ley los informes de la comisión de ordenación del territorio de la comunidad autónoma y de la autoridad del transporte de euskadi eta azkenik plana

aztertuz cojuak berak esan zuen parece recomendable que el anteproyecto previera algún criterio sustantivo que acompañase al ejecutivo en su tarea

cojuak berak esan zuen galdetu zuen bere buruari si no hubiera sido más conveniente recurrir al dictado de una disposición legal enteramente nueva

de continuar con modificaciones extensas o reiteradas

me van a permitir la licencia haciendo un símil sobre el comportamiento que he visto en los diferentes grupos políticos frente a este proyecto de ley se hizo en su momento un experimento

en una cámara a varios monos con una escalera en el centro de la cámara vacía y cada vez que un mono se subía a la escalera se soltaban unos rociadores de agua fría

sucedió que los monos cada vez que uno se subía a la escalera una vez que se habían dado cuenta se dedicaban a atizarle al mono que se subía a la escalera se fueron cambiando los monos

y poco a poco los monos fueron atizando a todo aquel que subía la escalera incluso aunque no saliera ya el agua fría llego un momento en que los monos no sabían por qué atizaban al que subía la escalera

pues un poco de eso está sucediendo con esta ley todos sabemos que es una ley que hay que cambiar todos sabemos que es una ley que podría y debería de haber sido

el resto de los grupos cuando a un mono nuevo se le ocurre subir a la escalera en vez de preguntarse por qué sube a la escalera

se dedican a decirle que no se puede cambiar ni una coma del texto a pesar de que es un texto atrasado a pesar de que es un texto que es perfectamente mejorable técnicamente y hoy vamos a retrasar diez enmiendas

que iban destinadas a mejorar algo que era perfectamente mejorable y no lo vamos a hacer simplemente porque nos hemos acostumbrado a tener un espacio institucional el espacio de las carreteras donde hay un mono que está encima de la escalera donde hay un mono que es el que gobierna el agua fría y el agua caliente mientras los demás monos

sin ninguna intención de cambiar la situación de cómo están las cosas y permítame la licencia lo digo porque con todo el respeto hablo de monos me lo van a entender los diferentes grupos aquí hay un mono que es el que está encima que

es el mono más listo porque no solamente abre la espita del agua fría sino que además abre el desagüe por el que se nos van todos los años cientos de millónes de euros en carreteras que algunas sirven y otras no

en la que vamos a gastar doscientos millónes de euros públicos

y mientras el mono que está encima de la escalera sigue allí gobernando y haciendo lo que quiere con las carreteras

ni siquiera enmiendan y a quien enmienda le rechazan esas enmiendas muchas gracias eskerrik asko becerra jauna ugarte andrea

y porque se ha empeñado usted en presentar una serie de enmiendas tampoco muchas pero creo que es oportuno hacer una valoración global de las mismas muy brevemente porque tampoco de verdad tampoco merece más la pena aunque

proponen que al prever esta ley una simplificación para la elaboración en el futuro

de apelar a una ley hacerlo exclusivamente con el informe previo de las diputaciones y de la comisión del plan general de carreteras sus enmiendas

y llega a sugerir varios de las enmiendas varios en la enmienda nueve es puramente técnica jurídica no es ni política es pura técnica jurídica

si se elabora un listado que justifique una modificación

y al tiempo que por mucho que haga un listado nunca será suficientemente exhaustivo como para que contemple todas las posibilidades y por tanto

habrá que hacerlo por ley cuando la lógica la lógica y la práctica dice que habría que hacerlo por decreto sin más

en un tema en el que los competentes sustanciales son las diputaciones

y el visto bueno de la comisión en la que participan las tres conjuntamente zuzenketen artean badago

son para empezar conceptos ya arraigados en la terminología que viene utilizando las diputaciones forales en su normativa que insisto

son conceptos y términos que los ha analizado en las sucesivas reuniones

de carreteras hace y en reuniones con frecuencia o en pleno o en ponencia esta comisión

y de su cohesión y coordinación donde se hace la política de carreteras

además de nombrarlas y catalogarlas en este parlamento en los quince días de enmiendas se nos ha ocurrido trastocar todo lo hecho porque nos parece que queda más chulo de otra manera a eso en mi pueblo de verdad a eso

no es que este parlamento no sea soberano en establecer la nomenclatura que desee que lo es para eso y para muchísimo más es que no han entendido el sentido de esta ley especifica

eskerrak ematen dizkiet y todo esto usted lo sabe

y aquí nos encontramos negándole todos los demás por tercera vez sus ocurrencias

sería romper con el pacto interinstitucional y trastocar de alguna manera la arquitectura institucional aparte y solo le voy a dar un ejemplo no voy a entrar en más detalles qué aporta donde la ley dice

decir como usted propone la red comarcal abarcará las carreteras que sin un flujo importante de personas o mercancías comuniquen comarcas vecinas sean del mismo territorio histórico o de territorios limítrofes con todos mis respetos aparte de que las carreteras solo pueden unir

añade un texto redundante que puede interpretarse equivocadamente las carreteras

y las personas y las mercancías que unen las carreteras lo son en el tráfico de personas y mercancías no porque las personas y las mercancías que por ella circulen lo hagan independientemente del tráfico salvo algún caso de personas que estén haciendo el camino de santiago en ese momento en conclusión si las cosas están bien y funcionan bien aunque siempre pueden ir mejor no necesariamente lo harán porque alguien cambie una definición o un nombre sin aportar más que redundancia porque cambiar por cambiar insisto es un y estas enmiendas parecen básicamente

cuando ocupen puestos institucionales en alguna diputación podrán establecer su técnica de la izquierda vasca para las cabeceras

de que si eso ocurre le pedirán a este parlamento que no modifique las definiciones que hayan establecido en cooperación con las otras diputaciones beste taldeek

tres cosas interesantes ha dicho usted señor tellería la primera es que la competencia en carreteras está en manos de las diputaciones sin duda

aquí no ponemos en cuestión eso aquí lo que ponemos en cuestión es que es este parlamento

y si tiene la competencia la tiene completamente también la de revisar el texto y si no somos expertos o expertas en la materia para eso están las comparecencias como la de la consejera

está la estructura y cómo funciona la cuestión de las carreteras que desde luego sí que le puedo asegurar que todas estas enmiendas tienen su sentido para ustedes a día de hoy para ustedes a día de hoy y porque esta ley viene del año mil novecientos ochenta y nueve las carreteras solo sirven para transportar mercancías

mire las definiciones y la ley que ha aprobado el estado el pp que yo no sé porque el pp en este tema calla habla de multifuncionalidad y habla de una serie de conceptos mucho más modernos dentro de la modernidad que se puede esperar del pp a nivel estatal

y se ha perdido una oportunidad de adaptar eso de adaptar eso

lo hemos resuelto en dos reuniones de cinco minutos no no en qué perjudica al anexo de carreteras que junto al nombre aparezca la categoría de la carretera para hacer más comprensible

en qué perjudica en qué cambia el marco competencial pero usted lo ha dicho la estructura competencial que tenemos está bien y funciona bien sí para el mono listo sí para el mono listo sí y para mí lo sorprendente aquí es que el resto de monos acepten el statu quo que plantea a día de hoy el pnv en la cuestión de las carreteras nuestro grupo no va a aceptar ese statu quo no lo va a aceptar porque somos un grupo de oposición y nuestra obligación es mejorar las cosas y proponer mejoras

no le voy a usted a retirar la palabra porque hoy voten en contra de nuestras diez enmiendas y mucho menos a la consejera por supuesto que no pero una oportunidad de hacer que este parlamento tenga ejerza su única competencia en materia de carreteras que es la de aprobar la ley del plan general de carreteras nunca

a dictarle al legislativo palabra por palabra lo que tiene que aprobar eso no es de recibo y es lo único que hemos puesto de manifiesto que se acepten o no estas modificaciones da lo mismo si el año que viene vendrá la cuarta modificación de la ley y luego vendrá la quinta y tenemos una ley del siglo pasado

siglos siguientes porque como la estructura institucional no se puede tocar no se puede tocar porque yo estoy seguro que en el nuevo estatuto que salga

el tema de las carreteras va a seguir exactamente igual exactamente igual porque hay mucho en juego y no precisamente político muchas gracias

eskerrik asko muy breve porque tampoco yo voy a insistir en que usted sigue la línea ideológica

y si uno analiza con un poco de detenimiento

de que no sirven para nada ni aportan nada y además las ha hecho al tresbolillo ha cogido el primer punto de la cojua y

ni ha pedido que la comisión comparecencias para que le expliquen en comisión la visión de otros no ha habido comparecencias en comisión ninguna no ha habido la consejera porque tenía que venir a explicar la ley eso correspondía pero nadie más no ha pedido

ni expertos en carreteras y luego ha cogido la ley del estado y ha dicho bueno en esto que se cumpla la ley del estado y en estas tres no al revés por ejemplo en funcionalidad

nos dice que en vez de funcionalidad digamos especialidad funcional y dirás eso y qué aporta qué

esa es mi pregunta a lo mejor el mono listo es otro distinto al que usted pensaba

hace el papel del mono que intenta mover la escalera solo para decir a los demás

pero mire también ha hablado de democracia sabe lo que es democracia que nadie le ha hecho ni caso el resto del parlamento

creo que no es así y yo invito a todos los parlamentarios a que lean detenidamente las enmiendas que usted ha presentado y explique qué

tráfico no habla de mercancías el tráfico incluye todo mercancías personas animales lo que usted quiera habla de tráfico y el de drogas también si quiere entonces deje abandone

ustedes no están aquí como caídos del cielo para explicarnos a los demás que somos viejunos y que estamos empeñados en mantener las cosas

los demás estamos aquí también para hacer las cosas bien y no porque hayan llegado o acaben de llegar ustedes aquí nos van a intentar explicar cómo se hacen las cosas las cosas cuando van bien mantengámosla como están e intentemos no zarandearlas eso es lo que ocurre muchas gracias

gracias señora presidenta señorías el grupo popular va a votar a favor de esta modificación de la ley

y regular el plan general de carreteras del país vasco así como coordinar el ejercicio de las atribuciones relacionadas con el mismo dentro de las competencias de las instituciones comunes una vez finalizado el plazo de vigencia del segundo plan de carreteras dos mil cinco dos mil dieciséis procede elaborar por parte del departamento del gobierno vasco

saben y conocemos es el departamento de desarrollo económico e infraestructuras el tercero plan

a la tramitación regulada por la ley de ordenación del territorio en la comisión del plan general de carreteras del país vasco integrada por el gobierno vasco y las tres diputaciones forales

absoluto respeto a las competencias de las distintas administraciones tal y como se contempla tanto en el estatuto de autonomía del país vasco como en la ley

de sus territorios históricos lo que habitualmente denominamos ley de territorios históricos

la modificación que hoy vamos a votar a favor nos parece oportuna porque hay

es la tercera modificación que se hace a esta ley se ha añadido

de la red la red complementaria se ha modificado algunos de los principios de la modificación de la red de carreteras vigente con el fin de coordinar en los términos de la ley reguladora del plan con la denominación de las carreteras de las provincias limítrofes y las legislación estatal de carreteras de dos mil quince y el real decreto

y autopistas de la red de carreteras del estado también a través de esta ley que hemos incorporamos el procedimiento de elaboración o que vamos a aprobar vamos

las variaciones que se han producido en la normativa de nuestra comunidad autónoma e instrumentos de ordenación del territorio de transporte e infraestructuras en el ámbito medioambiental con la ley

doscientos once barra dos mil doce por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas

se debe incorporar a este plan como es lógico y todos entienden pero eso se cuenta y se incorpora a esta ley

el régimen de revisión del plan con la pretensión de hacerlo más ágil

que aconsejan la adopción de nuevos criterios de ordenación de las vías de comunicación o de la evaluación de los trabajos y de las actuaciones realizadas por todo ello manteniendo el absoluto respeto a las competencias de las distintas administraciones nuestro grupo ha votado o va a votar a favor

hay quien ha venido a prostituir la actividad exclusiva de esta cámara y estamos viendo cómo se utilizan esta tribuna de atril de mitin de cámara electoral y lo que el día veinticinco no era posible hoy es posible y lo que no es posible hoy se está haciendo fuera y hoy se está debatiendo

por quien ha reclamado ahora mismo que es está cámara la sede de elaboración de los proyectos de ley y la tramitación de las leyes este es el mundo al revés

hay monos listos monos tontos y monos jetas eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

badaukagula yo viendo un poquito la tramitación de esta ley de verdad les digo que no encontraba ningún tipo

ningún tipo de enmienda entre otras cosas porque era una ley muy tasada muy técnica que venía muy trabajada por parte de las tres diputaciones forales y del gobierno que tiene sus objetivos perfectamente definidos en fin que es coordinar

definir cuáles son las competencias de cada una de las instituciones en relación a las infraestructuras viarias en fin renovar

no tenía ningún tipo de sentido el incorporar ningún tipo de criterio político pero al final

de esos padres que van a ver un desfile al patio del colegio y

hay que ver lo listo que es mi niño que el único que lleva el paso en condiciones es el mío eskerrik asko andueza jauna

mono tonto debajo de la escalera eta holakoak entzunda gero ba uste dut

expresando desde nuestro grupo que acogemos de buen grado un debate sobre la constitución de mil novecientos setenta y ocho porque consideramos necesario que se aborde ya una cuestión tan importante como el modelo de estado cuando han pasado más de cuatro décadas desde la aprobación de la constitución

década larga de profunda crisis institucional económica y social

no hay poder del estado que este al margen de una profunda crisis de legitimidad ejecutivos manchados por una corrupción rampante legislativos que son auténticos circos y un poder judicial subordinado al poder económico y financiero para nuestra coalición la actual constitución no es capaz de hacer frente a los restos que nuestra sociedad tiene por delante

social y territorial para los que no tiene respuesta por eso con naturalidad pero con toda la firmeza décimos que es momento

económicos y ambientales de la actual constitución que o bien se quedaron en papel mojado o bien ha sido incumplidos

y con derechos garantizar el derecho a la salud y a la educación pública gratuita y de calidad necesitamos asegurar el derecho a la vivienda o el derecho a un sistema público de pensiones decente frente a la actual constitución que no está sabiendo proteger una libertad de expresión bajo mínimos

salvaguarde las libertades políticas y extender los derechos civiles frente a una constitución que no ha sabido construir instituciones cercanas

necesitamos un marco constitucional capaz de evitar la corrupción y el clientelismo en la gestión de lo público

que impide que sean criticados que impide que rindan cuentas necesitamos

una forma democrática necesitamos una república estas fallas de la actual constitución todas ellas presentes desde el día uno de su aprobación

económica la ciudadanía y los trabajadores hemos cumplido con creces

algunos seguían llenándose los bolsillos a costa del resto y la patronal obtenía enormes beneficios y es que la constitución de mil novecientos setenta y ocho y la llamada transición democrática no fueron el cuento ejemplar de las crónicas de victoria prego de hecho

de debilidades en un país que intentaba sacudirse el yugo de una larga dictadura la constitución estuvo muy condicionada en exceso más de lo que incluso en aquel difícil contexto histórico era justificable sin embargo hay algunas cuestiones que creemos que es imprescindible

la primera es que en esa correlación de fuerzas gracias al empuje del antifranquismo del movimiento obrero de unos sindicatos combativos y de fuerzas de izquierdas en esa constitución se arrancaron conquistas hay quienes hoy hablarán del bienestar social del crecimiento económico del autogobierno y de las libertades que trajo la constitución del setenta y ocho y sí es cierto nosotros no vamos a negarlo las trajo

que se jugaron la vida para conquistar esos derechos y libertades pero los trajo en mucha menor medida de lo que debía y las trajeron

sino aquellos luchadores que he citado hoy defienden la inamovilidad de la constitución

pero no es menos cierto que la fuerte resistencia de las élites franquistas permitió preservar prerrogativas conservadoras en la constitución y no alterar la estructura de poder esto es muy evidente en el caso de la monarquía y de las elites económicas pero también afecta al poder judicial

y para lo malo de los aciertos y de los errores de aquel antifranquismo de aquel movimiento obrero de aquella izquierda que lucho y se jugó la vida por conquistar cada derecho y libertad

décimos que aspiramos a cambiarlo a tener más y mejores derechos más y mejores libertades por eso décimos con legitimidad que necesitamos un nuevo marco constitucional la segunda cosa que queríamos señalar

pensamos que lo hace con el interés de pintar un estado español completamente negro con el que confrontar una unidad de acción

que podemos coincidir en los problemas de carácter territorial y nacional que arrastra el texto

pero que no estamos de acuerdo en las soluciones nosotros pensamos que la constitución

y que precisamente por eso pensamos que hace falta una nueva nuestra propuesta política es clara pasa por una reforma o un proceso constituyente para un nuevo marco constitucional

que blinde y garantice derechos sociales y políticos pasa por una república en clave federal

pasa por la igualdad y la solidaridad interterritorial y entre diferentes generaciones esa es la base de la propuesta que nosotros ofrecemos pensamos que la solución no puede llegar del unilateralismo de ninguna parte

de rebelión inexistentes solo puede llegar nos guste más o menos de un acuerdo político para un nuevo marco constitucional y más democrático la tercera cuestión

es que efectivamente en euskadi el apoyo a la constitución en el referéndum fue muy limitado y con un resultado desigual en función del territorio y esto hay que tenerlo en cuenta no lo podemos obviar como tampoco podemos obviar que escuchar hoy al partido popular defender la constitución es una cosa curiosa

pedía el voto en contra de esa constitución la derecha decía que se había ido muy lejos cediendo

y en lo territorial y de ahí que tras su evidente derrota en aquel referéndum viniera la loapa el golpe de tejero o doctrinas restrictivas del constitucional reinterpretaban a la baja el contenido de la constitución y es que uno de los principales errores de la transición fue precisamente que no rompió con el franquismo

y del mismo modo una monarquía acostumbrada a los negocios oscuros

son lagunas democráticas que no pudieron abordarse hace cuarenta años como tampoco se ha evitado que esas élites económicas esos poderes fácticos sigan moviendo los hilos lo hemos visto en plena crisis lo hemos visto con los recortes sociales para rescatar a la banca lo hemos visto con las amnistías fiscales

podemos debatir por lo tanto sobre aquel proceso sobre lo bien o lo mal que se hicieron unas y otras cosas

a la de demócratas de toda la vida para mantener cotas de poder podemos debatir de cómo nos colaron la monarquía en un texto constitucional votabas el pack entero o no votabas

ese modelo vaciando de fondo la parte social de la constitución y reforzando la parte destinada a mantener los privilegios de las élites económicas y políticas para ejemplo la reforma

plantear una alternativa a la constitución vigente en estos momentos para ofrecer soluciones a los retos presentes y futuros de nuestra sociedad si creemos si pensamos

no es la norma constitucional que debería de tener el estado español

debemos decirlo claramente y plantear la necesidad de construir una alternativa si no nos quedaremos en la mera crítica histórica pero con la misma constitución y los mismos problemas sin solución porque transcurridos estos cuarenta años y ante una crisis del modelo del setenta y ocho

sino necesario de retomar lo que nos legaron quienes nos precedieron

continuar el esfuerzo de nuestros padres madres abuelos y abuelas que en un contexto de represión torturas cárcel y ausencia de derechos lograron conquistar los derechos de hoy haciendo de nuestro país un lugar mejor de lo que hubiera sido en ausencia de esa lucha

que garantice realmente la supeditación de la riqueza al interés general que consagre la igualdad real

independiente un marco constitucional que garantice la elección democrática de todos los cargos públicos incluida la jefatura del estado por lo tanto un marco constitucional republicano que consagre los principios de igualdad y fraternidad un marco constitucional que reconozca la realidad plurinacional del propio estado

adhesión de los pueblos y la ciudadanía eskerrik asko

la oportunidad que se nos da con la iniciativa de bildu de conmemorar el gran pacto de convivencia que ha posibilitado la mayor época de progreso y cohesión social que jamás se haya vivido en españa y también en euskadi

a todas las variantes golpistas y han sido unas cuantas que intentaron anularlo

que también quiso abatirlo el gran pacto sustentado en derechos y libertades que nos permitieron que todos también los vascos pudiéramos acceder al espacio más amplio de europa

si se sienten vulnerados un pacto que como defendemos en nuestra enmienda se mejore con blindaje de los derechos sociales que se enuncian en la actual constitución

de los distintos territorios y que propicie al menos un espacio de estabilidad y prosperidad como el vivido porque de lo que vamos a hablar hoy es de eso de la forma en que nos organizamos de las mayorías y reglas que acordamos de la forma en que se acuerdo resulta útil a la ciudadanía y de la forma que podemos adaptarlo a las nuevas realidades sociales demográficas tecnológicas

europeas el socialismo ha estado en todos y cada uno de esos acuerdos en los que se han expandido derechos y libertades y que siempre siempre

de las formaciones que tenemos presencia hoy en esta cámara solo los socialistas y el partido comunista podemos decir que estuvimos en el sí a la constitución

el sí a la constitución del mil novecientos setenta y ocho y en el sí al estatuto

con una lectura tan crítica de lo que supone la constitución vigente reconociendo que tiene lagunas que tiene fallos y que es necesario reformarla porque de ese apoyo a la constitución solo su partido y el nuestro pueden presumir en este momento

y de eso trata la constitución no solo de números porque las matemáticas son ciencia exacta pero la política basada en números no lo es y esta iniciativa de hoy

que lo que busca es de nueva confrontar legalidad y legitimidad mayorías

se nos dice que la constitución fue refrendada por el treinta por ciento de los vascos y esto dicho así sin más es tan falso como si el voto en contra que alcanzó casi el seis por ciento

de blas piñar que defendían el mismo voto a los socialistas no se nos ocurre llegar a la conclusión de que esas dos fuerzas pidieran el voto en contra por las razones que ahora señala bildu salvo que esos votos los quiera cargar la izquierda abertzale a su mochila o tan falso como decir que la abstención que pidió el pnv

era totalmente atribuible a ese partido y que se puede trasladar a un argumento de falta de legitimidad si analizamos todas las elecciones toda la participación podríamos llegar a la conclusión de que tampoco el estatuto de gernika fue refrendado por el

que la mayoría de los gobiernos que ha habido en euskadi en treinta y ocho años tampoco han tenido el respaldo de la mayoría de los vascos y que por derivada en términos de legitimidad

o tan falso como negar el hecho de que la mayoría de los representantes vascos en las cortes avalaron la constitución porque solo uno de los veintiuno se opuso y que su condición de representación popular no puede ser negada porque por la derivada también no habría tenido legitimidad alguna

porque no fue refrendado por la ciudadanía tan falso como si no entendiéramos los momentos los argumentos y las razones que movieron a todos

del nacionalismo como si negáramos una forma de entender a euskadi distinta de la nuestra porque nos agarráramos a unas palabras

y que leo textualmente el pnv acepta la unidad de españa la integración del país vasco en esta unidad desde las peculiaridades históricas y jurídicas que hemos mantenido durante tantos siglos no me lo estoy inventando

lo que ocurre es que los socialistas sabemos leer y entender por qué estas palabras como sabemos leer y entender por qué existe la constitución porque entendemos que esta sociedad es plural y lo que hagamos debe ser capaz de articularlo y gestionarlo el debate es tan falso

desencadenó una ofensiva terrorista brutal después de que la ley de amnistía hubiera vaciado todas las cárceles y que desde esa convocatoria hasta el referéndum en solo dos meses eta asesinó a veintinueve personas cinco de ellas

la abstención fue más alta que en euskadi o que sin embargo en navarra

fue similar al resto de españa la participación porque tergiversar los números tiene estas cosas provoca debates falsos

sobre supuestos falsos de quienes pretenden engañarnos con las matemáticas es el debate que plantean quienes hacen de la participación reglada un lema

relativizan una ínfima participación del trece por ciento en consulta sin reglar que duran una semana

pero con un amplísimo altavoz mediática y esas sí son buenas para ustedes una trampa planteada por quienes tuvieron que asumir la constitución a la fuerza tras haber intentado derribarla sin éxito una trampa en la que cae de forma sorprendente

que se pretende deslegitimar lleva ya más de tres décadas gestionando noventa y cuatro de cada cien euros en este país una trampa en la que no se reivindica con claridad

como un gran acto de afirmación democrática pero el debate que se nos ha propuesto es una buena ocasión

vemos en este país personas que en su vida diaria se relacionan con otras personas que piensan diferente

que hay quienes seguimos recordando a quienes hicieron posible y cómo lo hicieron la constitución del treinta y uno el estatuto del treinta y seis a aquellos milicianos y gudaris que con toda la generosidad del mundo sin rencor y sin pedir cuentas a nadie defendieron la legitimidad de aquellos pactos

quienes vieron que hace cuarenta años se reabría el camino de la dictadura

y recordamos también a quienes quitaron la vida por hacer que ese espacio compartiera

no se anulara y hoy se volverán a esgrimir mayorías

y nosotros desde el grupo socialista defendemos el valor del pacto que nos hace a todos ser lo que somos y debatir lo que debatimos incluso

queremos defender el valor que ha tenido y tiene esta constitución con sus defectos con sus fallos y defiende su mejora y su reforma

y para que se mejoren las relaciones entre los distintos territorios de españa es verdad que ahora hay pocos mimbres lo decía ayer en una charla el exlehendakari

el panorama como para ruidos casi mejor que nos quedemos como estamos

porque probablemente les interese hacer de esto un capítulo más de propaganda y de suma del acuerdo de bases que han pactado ustedes con los señores del pnv eskerrik asko pastor jauna

emendakin hartan se devuelven a las regiones forales de álava gipuzkoa navarra y bizkaia sus instituciones y poderes

manteniendo el rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido ostentando sus antecesores las regiones forales mencionadas que así lo decidieren podrán formar un único ámbito territorial creando de común acuerdo las instituciones necesarias y conservando cada una de ellas las facultades que le sean propias y considere oportuno reservarse

que transitó del congreso al senado que si se aprueba o no se aprueba

como todo y hay interpretaciones y hay actuaciones concretas

eskerrik asko presidente andrea señoras señores consejeros señorías

básicamente hoy estamos en este debate porque el resto de grupos

a todos ustedes les sobra esta constitución y quieren otra o algunos reformarla otros cargársela otros crear

responder al debate tal y como lo han planteado tanto por escrito como después de sus intervenciones a resultas de lo que hemos tenido oportunidad de conocer

no fue respaldada por los vascos y que no reconoce pisotea nuestros derechos como pueblo

elkarrekin podemos en una actitud ya por todos conocida también

una generación no puede atar con sus leyes a generaciones futuras el partido socialista también quiere otra constitución porque hace falta para que convivan los territorios y el partido nacionalista vasco básicamente dice ya lo mismo exactamente lo mismo es indistinguible el discurso del partido nacionalista vasco del de bildu conviene comenzar recordando porque aunque vivamos en tiempos confusos y en los que la pos verdad va abriéndose camino a marchas forzadas y a veces parece que incluso lo hace

con cierta fuerza que la constitución sí fue aprobada en el país vasco

porque si no parecería que la mentira es verdad

dijeron que no es un argumento extraordinariamente endeble muy interesado

rotunda la abstención en función de si me interesa o no

y tan endeble que cabría preguntarse si por lo tanto

los resultados electorales en navarra sí avalan la constitución o incluso en álava

la avalan por lo tanto la constitución sí fue aprobada en el país vasco sí fue aprobada en la comunidad autónoma de euskadi sí tiene el respaldo de los vascos tiene plena legitimidad

dos mil cinco no tiene legitimidad y no es aplicable en el país vasco señor egibar porque la abstención fue la que fue en el año dos mil cinco para ratificar los tratados de

y que incluso el voto fue negativo por encima de positivo en euskadi la constitución europea no tiene legitimidad en euskadi señor egibar de verdad que el partido nacionalista vasco defiende eso

no son pisoteados por la constitución precisamente son nuestros derechos los que se amparan en la constitución los derechos lo tienen los ciudadanos los tienen los individuos

que pretenden convivir en el espacio público en una sociedad plural y son las normas

nuestra convivencia precisamente la constitución española que como bien se ha recordado antes sufrió innumerables o importantes embates entre otros un intento de golpe de estado

también fue capaz de sobre ponerse singularmente en euskadi al embate de una organización terrorista

pero no hay que olvidar también que precisamente fue la organización terrorista eta el legado del franquismo que más ha perdurado en democracia

si algún franquista también hubo y esto no entraré en detalles señor urizar pero que algunos franquistas rápidamente se reconvirtieron en nacionalistas en euskadi

purezas de sangre o trayectorias particulares ojo que tienen muchos protagonistas y tiene también muchos nombres y apellidos

el argumento adanista al que nos tiene también acostumbrados podemos también se cae por su propio peso las constituciones tienen vocación de permanencia

que reconocen derechos obligaciones que establecen como se organizan las comunidades complejas las comunidades políticas complejas

en los estados unidos de américa en alemania los franceses

si alguien pretendiera como podemos no sé si con el sentido

de en relación con las generaciones establecer que cada veinte o treinta años hay que hacer un nuevo marco de convivencia estaríamos en esquizofrenia política de difícil resolución además de la inestabilidad obvia que establecería para nuestras sociedades para poder desarrollarnos y evolucionar

en esto no deberíamos de discrepar y deberíamos de estar unidos es verdad que

son compartidos por el partido popular pero no podemos estar de acuerdo con el argumento del partido socialista que pretende decir que

se tiene que dar respuesta a un estado descentralizado que es lo que hace la constitución española para que la administración para que la gestión

no de una manera singular lo hacen todas las constituciones en términos de derecho comparado de nuestro entorno al menos de occidente en esto no somos diferentes

lo que sorprende singularmente es esa copia esa unión ya indestructible entre el partido nacionalista vasco y eh bildu en esta materia sorprende no porque la desconozcamos sino porque ya no hay maquillaje posible ya ustedes han prescindido del maquillaje y en esta escalada continua hacia no sé qué montaña ustedes ya van

agradecemos la transparencia y la claridad con la que hablan con la que usted duda incluso del carácter democrático de la constitución o del sistema del que nos hemos dotado cuando usted habla de una pseudodemocracia sorprende porque hoy precisamente estamos aquí sentados

tenemos consejeros tenemos un régimen foral con sus diputaciones con sus asambleas tenemos ayuntamientos gozamos de un estatuto

gozamos de un régimen de libertades que nos ampara que permite no solo nuestra convivencia

etcétera etcétera etcétera y sorprende que venga del partido nacionalista vasco cuando son ustedes los que más se han beneficiado políticamente de la constitución española

cabe mayor deslealtad que la que expresa el partido nacionalista vasco cada vez con menos maquillaje en relación con las normas de las que nos hemos dotado para convivir en este caso con la constitución española

en cualquier caso y para terminar porque creo que tampoco da para mucho más esto quiero decirles una cosa

tiempos complejos tiempos en los que las posverdad

parece que gana espacio y parece que va colonizando no solo espacios de la política sino también sociales

impulsados por independentistas en el caso concreto de cataluña que parece que el estado de derecho sufre o que el estado de derecho se tambalea y con él la constitución

está también haciendo quebrar la confianza en esas instituciones y en esas normas de convivencia

que nos han permitido sí progresar y evolucionar como nunca en nuestra historia y estoy pensando en el conjunto de españa pero singularmente en el país vasco y les quiero decir una cosa

pero también con mucha rotundidad ni el populismo de podemos ni de vox ni el independentismo de bildu ni del partido nacionalista vasco van a conseguir subvertir el orden institucional y cargarse la convivencia entre españoles y entre vascos esto

es la cuestión que nos motiva ni mucho menos cuando cuestionamos la actual constitución al señor pastor me voy a dirigir en primer lugar porque

el partido comunista decidió y apoyó y pidió el voto masivo para la constitución de mil novecientos setenta y ocho efectivamente a mí me sorprende que esto

porque al partido comunista no le quisieron escuchar jamás el partido comunista hace diez años

públicamente que daba por roto su parte del pacto constitucional no por capricho no por un cambio ni por una

consideramos que aquel pacto constitucional está roto la parte que fueron conquistas de derechos y yo en mi intervención

para nada se han saltado por todas partes no se han respetado en cambio las partes

son las que han permitido mantener un sistema favorable a las élites económicas

parciales han sido siempre en contra de los de abajo y a favor de los de arriba y por lo tanto la posición de nuestra coalición

que nuestra izquierda política mantiene ya desde hace una década ni consideramos que vivamos en el mismo régimen

y sobre todo sería faltar al respeto a los demócratas que lucharon por conquistar derechos pero no vivimos en el marco constitucional que nos parece

y eso es lo que nosotros hemos venido a plantear y ese es el planteamiento de nuestra intervención esas son las razones por las que nosotros defendemos que debe haber un nuevo marco constitucional y no seremos tampoco nosotros

de una posible vía de reforma de la constitución aunque yo particularmente creo que necesitamos un proceso constituyente participativo

en cualquier caso creo que el señor sémper ha dicho una cosa que tiene parte de razón dice algunos se quieren cargar la constitución otros quieren reformarla y otros quieren una nueva

nosotros planteamos una nueva constitución y usted dice que el debate democrático sobre el marco de convivencia genera inestabilidad

usted ha dicho eso señor sémper cómo el debate democrático sobre el marco constitucional puede generar inestabilidad

pensamos que la constitución que tenemos no es la que necesitamos

y ustedes tienen una actitud absolutamente inmovilista no quieren mover nada están contentos como están las cosas

el que genera problemas también en el campo territorial es ese inmovilismo el que genera inestabilidad

es la propia actitud de las instituciones la que ha quebrado la confianza de la ciudadanía en las instituciones amparada por un marco constitucional que no es capaz de dar respuesta a eso y por eso planteamos que necesitamos un nuevo marco constitucional

tienen vocación de permanencia siempre que sean renovadas y la nuestra

a los de abajo y a la clase trabajadora por eso nosotros pensamos que es el momento que es el momento de iniciar el debate

podemos debatir y tendremos diferentes puntos de vista sobre cómo fue de la llamada transición pero sobre todo y al hilo del debate que se traía hoy a nosotros nos interesa poner sobre la mesa que lo que necesitamos es un nuevo marco constitucional que dé respuesta a las necesidades que tenemos porque el que tenemos

solamente se van a agravar los problemas sociales y territoriales ustedes dicen que tenemos un régimen

nosotros ya he dicho que en la constitución hay derechos que han sido conquistados y que nosotros no despreciamos existen

pero también hemos comprobado como esos derechos son ninguneados y la constitución no es capaz de defenderlos y solo me referiré

el de huelga y el del trabajo dónde está el derecho al trabajo en este país

bueno vamos a ver si seguimos haciendo un poco de crónicas de estas del abuelo cebolleta tan del gusto de algunos parlamentarios

que no se permitió la participación del pnv y del partido socialista popular y probablemente aquello fue un error

yo voy a leerle un texto durante la discusión de las enmiendas

otras concesiones como la disposición adicional primera que no es la que el pnv quería pero al final se aceptó un texto con el capital reconocimiento de los indefinidos derechos históricos

fue una de las mejores cosas que hicimos porque por una parte digo que sí y por otra digo que no

votar que no he hice lo que tenía que hacer una jugada política para mantener algo en la constitución

y aprovecho las dos vías pero el hecho es que sobre esa disposición votaron a favor es verdad

que si ustedes por una parte me están diciendo que no votaron la constitución porque no se veían suficientemente representados en la figura de los derechos históricos que aparecían en esa disposición adicional primera cómo es

para justificar el acuerdo de bases para el autogobierno si no valía para aprobar la constitución y sí vale para cambiar y hacer otra nueva y tirarla por tierra eso es un poco incoherente no tiene mucho sentido

si aquello no valía porque estaba mutilado cómo es que esa definición mutilada le sirve a ustedes ahora para justificar una voladura controlada

no tiene ninguna lógica nosotros no lo vemos desde luego lógico en absoluto yo voy a coincidir con el señor hernández en que efectivamente tenemos una coincidencia plena en que pusimos en valor aquel gran pacto de la transición que no fue una renuncia su gente la nuestra los herederos de la legalidad republicana

y cedieron mucho probablemente más que nadie fueron los más generosos y siempre han defendido la constitución y ahora es verdad coincido con usted en que es momento de renovarla de cambiarla de mejorar determinadas cosas que no se han puesto en marcha suficientemente o que han fallado y luego pues yo me alegro de haber visto la tribuna una especie de san francisco de asís

bendiciones con un buenísmo político absoluto que yo le agradezco por el tono pero en fin

soy el máximo defensor de la democracia igual que usted pero usted habla de democracia como un concepto abstracto

que la democracia aun llevando hasta lo más radical de sus interpretaciones tiene reglas y tiene procedimientos que hay que respetarlos incluso para cambiarlos esa parte ustedes se la saltan la saltan la obvian la evitan con lo cual

la lógica del argumento que pretenden utilizar ese buenismo qué hay de malo en votar que dicen también los nacionalistas catalanes nada usted siga las reglas establecidas

y son las que nos permiten vivir en convivencia si ustedes dinamitan todos los consensos apelando eso sí cosa que hay que agradecer con buenos modos y buenas maneras pero hacen trampa
en el argumentario el argumento se cae por sí solo eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

aquí hay mucho demócrata en contra de sus convicciones mucho demócrata en contra de sus convicciones eta gaur egun ere

non euskaraz lehen aipatu dut esaten da la mayoría de la ciudadanía de la comunidad autónoma de euskadi no respaldó la constituían en el referéndum de mil novecientos setenta y ocho

la mayoría treinta coma ocho señor pastor usted me está pidiendo mayorías cualificadas para reformar el estatuto me dice que no se puede reformar el estatuto si no hay una participación

y una mayoría absoluta de parlamentarios aquí y usted se atreve a decir que con el treinta coma ocho por ciento la ciudadanía vasca respaldó mayoritariamente no no se lo cree nadie la constitución española que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española

la unidad décimos desde la imposición

desde la obligación suponía y supone construir el estado español desde una base antidemocrática y además históricamente falsa porque dicha unidad no fue ni es consecuencia de la libre adhesión y voluntad de los pueblos y el tercer punto

de forma yo creo que diversa para intentar tener puntos de convergencia una generación no puede sujetar con sus leyes a las generaciones futuras y en este sentido y tras cuarenta años de vigencia de la actual constitución

o proceso constituyente que se realice ha de dar respuesta a los retos de blindar los derechos sociales garantizar las libertades y reconocer y articular el carácter plurinacional y plurilingüe del estado en una clave federal y o confederal
amaitu mesedez tenemos distintas visiones pero hemos federal y o confederal teniendo que incorporar al texto constitucional

eskerrik asko presidente andrea intentando ir muy telegráficamente señor

de aquí pedagogía y tampoco tengo una singular vocación didáctica pero se lo voy a volver a repetir

allá por el siglo dieciocho se resolvió esto de los territorios y la ciudadanía está superado entiendo que ustedes en su concepción de la vida y de la política pues todavía viven anclados prácticamente en el medievo político pero ya se resolvió sabe y entonces lo que impera hoy al menos en el mundo desarrollado en occidente allí donde la gente pretende convivir

de acuerdo de ser capaces de administrar nuestras diferencias para

porque son imposibles de conciliar porque las emociones son tantas como ciudadanos existen lo que las normas hacen es permitir amparar esas emociones para que no choquen

entiende la pluralidad de la sociedad a la que se dirige y ampara sus libertades ampara sus emociones para que no choquen para que todas puedan ser expresadas en el espacio público para que se

nos lleva a la guerra y al enfrentamiento nos lleva también al terrorismo eso es lo que quedó resuelto en españa como nunca en historia con la constitución de mil novecientos setenta y ocho a pesar de que hubiera quienes intentaron subvertir el orden constitucional a través de un golpe de estado

y me pregunta usted qué es democracia no solo es votar también se votaba en el franquismo eso era democracia absolutamente no la democracia

es el encuentro de muchas circunstancias y muchos factores claro que el voto es una singularidad que tienen los régimenes democráticos pero también es la observancia al ordenamiento jurídico y a las normas de convivencia lo contrario es otra cosa

o la ley del populista de turno que gobierna y que es donde las normas las malea en función de sus propios intereses particulares

en otras sociedades y otros régimenes políticos yo no creo

inestabilidad lo que decía es que el adanismo generacional sí genera inestabilidad es que si a un norteamericano usted le plantea va allí con un discurso o a un alemán

en la década de los cincuenta resulta que hay que cambiarla transformarla de arriba abajo porque ya no sirve o a un francés claro que las normas fundamentales están sujetas a modificaciones de reformas por supuesto que sí

se puede permitir porque eso sí que genera inestabilidad es poner patas arriba el entramado constitucional de sociedades modernas en función de si uno ya

ser revisionista con lo que hicieron sus padres esto es lo que intentaba compartir con usted y esto es una de las funciones de fondo sobre las que discrepamos por qué existe el artículo

compruebe usted constituciones de nuestro entorno compruebe constituciones de nuestro entorno pero no se vaya muy lejos quédese en europa

de la unidad indisoluble de sus naciones como hablan del papel democrático del ejército en defensa también de esa unidad esto no es algo que se inventó el constitucionalismo español en el año setenta y ocho es algo que existe a las democracias consolidadas de todo nuestro entorno

claro que la ley no es inmutable pero si ustedes no van ni tan siquiera a los foros que se constituyen para cambiarla en el congreso de los diputados

no van han dado la espantada qué tipo de reforma quieren emprender ustedes o qué debate sereno y

ustedes quieren otra cosa ustedes quieren de la mano de bildu claro que les sobra la constitución

que es dividir antinatura a euskadi en relación a españa

unos nacionales y otros ciudadanos y hay una sorprendente y para terminar ya

los argumentos se pueden compartir o no pero deben de tener cierta solidez

de los años en los que hemos estado debatiendo en la ponencia de autogobierno

en la disposición adicional primera de la constitución y han dicho y usted lo ha defendido en numerosas ocasiones y ustedes han defendido en numerosas ocasiones que eso les ampara y les habilita para

euskadi y hoy aquí nos dice exactamente lo contrario el argumento no se puede estirar como un chicle hasta que a uno parezca que le da la razón están jugando ustedes con fuego pero no están jugando con fuego en relación con un hipotético tribunal no se vaya ahí no hace falta

que es la convivencia plural en euskadi de la capacidad que hemos tenido los vascos a lo largo de estos cuarenta años a pesar de la existencia de eta y a pesar de la existencia de quienes justificaban a eta hemos tenido la capacidad de convivir y de pretender ser libres

sea la misma y ahí no nos pondremos nunca de acuerdo porque las emociones como usted convendrá conmigo son absolutamente subjetivas en lo que nos tenemos que poner de acuerdo son unas normas que nos permitan convivir que a usted le permitan convivir con comodidad y vaya si vive cómodo el partido nacionalista vasco

y del partido popular que les permita convivir con normalidad y con naturalidad y con libertad

y esa pluralidad y esa convivencia serena y sensata es la que ustedes de la mano de bildu están poniendo en riesgo y claro que van a tener ustedes al partido popular enfrente

regidor de bakio con el pnv durante dieciséis años y condenado a dos años y seis meses de prisión por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración gonzalo riancho alcalde de muskiz y luego concejal del pnv condenado a siete años de inhabilitación

alcaldes del pnv declarados responsables de la gestión ineficiente de la sociedad

que supuso un agujero de cuatro coma uno millónes de euros caso purines más de diez millónes de euros en ayudas públicas despilfarrados y tres políticos del pnv condenados caso margüello

personal de un consejero de salud del pnv ayuda a forrarse

un modelo de filtración selectiva de exámenes que vulnera la igualdad de oportunidades favoreciendo

caso de miguel aun sin sentencia pero con un alegato del fiscal con consideraciones como la de la existencia de una trama organizada para cobrar comisiones y articulada en torno a personas cuyo nexo común el pnv o la de la utilización de prácticas más propias de sicilia

mínimamente serio estos son algunos de los casos que ilustran una política vasca donde el clientelismo es una forma de entender las instituciones

de este parlamento del siguiente texto el parlamento vasco desprecia cualquier conducta que conlleve una mala utilización del poder público con el objetivo de conseguir

ocultamiento o protección de este proceder toda una declaración de intenciones por parte del pnv con una huida hacia delante en toda regla y que parece querer eludir el debate

una proposición no de ley en la que únicamente se insta al gobierno vasco a encargar a la universidad del país vasco un estudio detallado sobre la corrupción y el clientelismo en euskadi y es que en dicho estudio

e impacto negativo en el empleo la recaudación fiscal la competitividad de nuestra economía la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos aspectos que hemos visto reflejados en casos como margüello de miguel o las ope de osakidetza pedimos también que contenga un conjunto de recomendaciones para la erradicación de las lacras políticas y económicas que suponen la corrupción y el clientelismo en euskadi es importante que la ciudadanía visibilice los efectos del clientelismo

que suponen quebranto en el erario público son una muestra de cómo la corrupción enriquece a unos pocos

para elkarrekin podemos la lucha contra el clientelismo como modelo de corrupción predominante en euskadi es base de la regeneración democrática la decencia política y la igualdad de oportunidades y para erradicarlo todos los medios materiales y personales posibles con el fin de identificarla juzgarla y condenarla el juicio del caso de miguel ha colocado el clientelismo en la agenda política y mediática de euskadi

de instrucción conocemos las conclusiones del informe del caso de miguel

ni para la fiscalía ni para la opinión pública parece haber dudas esta red clientelar tiene un denominador común su relación con el pnv en este país ser

es un acto de heroísmo invertir ilusión conocimientos y recursos en un proyecto que no va a estar avalado por un jeltzale es poco más que querer

ese partido amigo de los acusados ha demostrado también ser amigo de la impunidad de no investigar de hacerse el que no quiere oír un partido amigo de los imputados pero no de los fiscales

amigo de las empresas que se reparten el negocio de los comedores escolares pero no de las familias que tiene que pagar los sobrecostes de este oligopolio amigo de quienes tienen un determinado carnet pero no de miles de personas opositoras a las que las filtraciones de las respuestas de los exámenes de las ope no les fueron facilitadas

un amigo del amiguismo del clientelismo que permite que en euskadi algunas personas por su relación con el pnv tengan más oportunidades que otras

ha sido escandaloso escuchar de boca del fiscal jefe

que externalizar la investigación conduce a la misma al fracaso que en este país no tenemos una verdadera policía judicial

las investigaciones pierden vigor refiriéndose al gobierno

el fiscal se negó a que las pruebas incautadas por el caso de miguel fueran trasladadas a la base central de la ertzaintza en erandio

quién le pone coto a las investigaciones de la ertzaintza en temas de clientelismo en euskadi

explican que hoy en este parlamento al igual que el pasado veintisiete de septiembre el pnv vaya a oponerse a que las instituciones de las que se aprovecha dejen otra vez a otro lado esta iniciativa quiere que la ciudadanía vasca pueda sentirse defendida y protegida por su gobierno esta iniciativa quiere

ningún tipo de impunidad con el clientelismo y que se rechaza cualquier tipo de corrupción esta iniciativa quiere que este gobierno deje de estar callado

el impacto negativo que actividades como asociación ilícita

prevaricación cohecho falsedad documental malversación continuada de caudales públicos tráfico de influencias tienen sobre el empleo la recaudación fiscal la competitividad de nuestra economía en la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios porque en euskadi

y eso tiene que saberse mila esker eskerrik asko macazaga andrea

vuelve a este debate a recordar no lo que hace no lo que dice perdón si no lo que viene haciendo desde hace ya un tiempo

plantea la iniciativa con la exigua justificación de que en el momento del registro se habían conocido dos sentencias sobre sendos casos que un gobierno socialista había puesto ya en manos de los tribunales y sobre otro que está pendiente de que los jueces decidan porque un gobierno socialista lo puso en manos de la fiscalía las sospechas que tenía y que en lo referido a las responsabilidades políticas

también con nuestra participación por eso sin perjuicio de cuantos estudios pueda pedir esta cámara a quien quiera pedirlos lo importante es que hoy nos ratifiquemos

el rechazo a cualquier forma de corrupción no solo como forma de enriquecimiento ilícito si no por el uso del poder público para lograr ventajas de forma ilegal

que comenzamos hace dos legislaturas del acceso a la información sobre contrataciones públicas y la apelación al conjunto de las instituciones para que colaboren ante cualquier denuncia o ante cualquier sospecha de mal uso del dinero público que es el dinero de la ciudadanía y poco más puede añadir este grupo a partir de estas posiciones porque llevamos en este curso un ritmo mensual del mismo debate al que no le quitaremos la mínima transcendencia pero en el que es evidente que no habiendo nada nuevo los argumentos de unos y otros se repetirán

que dije en septiembre lo que dijo mi compañera natalia rojo en octubre lo que dijimos la legislatura pasada y lo que dijimos e hicimos cuando todos y cada uno de los asuntos de los que hablamos todos

que no dejó pasar una sola sospecha sin contraste político y penal lo puso en manos de la justicia habrán cambiado los gobiernos habrá pasado el tiempo

el posicionamiento político en su momento fue claro no tenemos ni medio problema en reiterarnos cuantas veces se quiera

y en las conclusiones y recomendaciones en las que participamos pero sí nos parecía oportuno apelarnos a nosotros mismos a esta cámara porque cuando se fueron destapando loas asuntos sospechosos que hoy de nuevo se traen a colación

que fueron pioneras en españa y que nos situaron en el nivel más exigente de transparencia internacional en cuanto a gobierno abierto

y como parlamento introdujimos una serie de recomendaciones añadidas que se han ido aplicando por seguir hablando de los mismos casos que hace siete años cuando la novedad está en la actuación judicial nada más es la única novedad los casos son los mismos

la novedad es que la justicia está actuando en lo que no hemos avanzado desde entonces

que esté al nivel de las prácticas que adquirió aquel gobierno socialista

se está trabajando en ponencia y lo que es de esperar es que pueda concluir con un consenso tan amplio al menos

en las que expresamos voluntades e intenciones como nos escucharán cada vez que se nos presenta la ocasión el grupo socialista pretende que está ley esté tan a la vanguardia como las prácticas señaladas y que permita seguir el rastro de cada euro

sea de manera directa concertada o subcontratada en forma de subvenciones ayudas o becas esa es la voluntad que venimos no explicando sino practicando desde las distintas responsabilidades que hayamos tenido como gobierno y como grupo parlamentario y es en la que nos queremos ratificar hoy nuevamente

de su proposición no de ley se puede vislumbrar el fundamento de la misma el escaso fundamento

dice mucho ante qué tipo de iniciativa nos encontramos

ez la justificación de su iniciativa

un apriorismo discutido y discutible sin mucha evidencia empírica que lo soporte pero tampoco hace falta

recitar un rosario incluye

como ejemplo de clientelismo le falta muchísimo rigor a su exposición tendría que decirle no sabía yo que había cardiólogos

su secretario general lander martínez ya lo decía hace tres años sin haber ninguna sentencia de las que usted ha citado encima de la mesa

en euskadi hay una lacra mucho más asentada que la corrupción y es el clientelismo político

legal de corrupción decía que es una forma legal de corrupción en el que las adjudicaciones y las concesiones se dan a empresas afines a las

ya lo decían por lo tanto no necesitan justificar nada absolutamente nada de forma inopinada meten en el mismo saco las sentencias del llamado caso margüello la planta de purines de carranza y las previsibles conclusiones del llamado caso de miguel

tengo que añadir que se tratan de y cito textualmente de su iniciativa lo cito textualmente tramas clientelares del partido nacionalista vasco ya lo tienen

en qué quedamos señores de podemos si el clientelismo es una forma

saben ustedes de qué estamos hablando cuando hablamos de redesclientelares porque usted ha incluido en esa olla olla a presión todo tipo de cuestiones que nada tienen que ver entre sí habrá que ir definiendo conceptos o es que todo les da igual lo mismo da que da lo mismo

a las que hacen referencia lo mismo les da una gestión fallida que irregularidades que redes clientelares

en el mismo saco todo lo meten en el mismo saco cuando las circunstancias y los hechos que se juzgan

todo para avalar su tesis prefijada de antemano y que vincula al pnv con oscurantismo con tramas y con redes

yo no voy a decir que vivimos en el oasis vasco no lo voy a decir porque tampoco pienso que españa y francia

ahora bien tienen ustedes una obsesión insana diría yo de igualarnos con lo que pasa en valencia en madrid

sino también el panorama estatal en el que se han instalado ustedes y en ese marco nacieron en ese marco crecieron y florecen como

mantienen un marco de juego que nos iguala a la baja en esto también la corrupción desafortunadamente

a esa bandera porque no tienen otra no tienen otra pasen de la protesta a la propuesta

reales no como esta que es más tengo que decirlo efectista que efectiva vayamos a

se insta al gobierno vasco a encargar a la universidad del país vasco un estudio detallado sobre la corrupción clientelar en euskadi que informe de su volumen

negativo nada más y nada menos que en el empleo la recaudación fiscal la competitividad de nuestra economía la igualdad de oportunidades y la calidad en los servicios públicos el citado estudio dicen ustedes que será presentado en esta cámara en un plazo no superior a nueve meses y contendrá un conjunto de recomendaciones para la erradicación

sociales políticas y económicas de verdad señora macazaga se cree la propuesta

muy poco margen de tiempo para tan ambiciosa y magna tarea

vamos al asunto mollar de esta iniciativa el clientelismo se ha descrito por los sociólogos y por los politólogos

de baja intensidad con apariencia de legalidad y por lo tanto muy difícil de detectar sí eso es así veo muy difícil que haya estudios concienzudos y rigurosos primero que la detecten y segundo que efectivamente que nos digan qué incidencia tienen en el empleo en la recaudación fiscal

la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos de verdad se lo cree señora macazaga por cierto qué departamento del gobierno será el encargado

tan ambicioso estudio porque es ambicioso y a su vez transversal será hacienda será gobernanza publica será desarrollo económico

abarca esta amplia su espectro que tiene que

la que la encargue no guk esaten duguna

guzti guztia tenemos trabajo por delante hay una ponencia constituida al efecto pongamos todos de nuestra parte para aprobar esa ley por otro lado eh bildu ha presentado recientemente en el parlamento una proposición de ley para la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción

sobre su toma en consideración hay una nueva oportunidad para el debate debate efectivo con propuestas con enmiendas con medidas que incidirá

señora presidenta egun on guztioi bien voy a intentar a ver si no soy muy superficial y consigo dar evidencias empíricas de lo que estamos hablando contrato para la concesión de un centro de día de una residencia en balmaseda y en arrigorriaga por importe de cuatrocientos millónes de euros por un plazo de cuarenta años por parte de la diputación foral de bizkaia adjudicataria residencias nostem presidenta de esta sociedad

de obras por importe de más de quinientos millónes de euros en instituciones gobernadas por el partido nacionalista vasco

josu bergara etxebarria el que fuera diputado general de bizkaia del partido nacionalista vasco javier ruiz moreno

quienes elaboran el informe que sustenta la adjudicación miren josune solabarrieta cuñada de iñaki anasagasti y hermana de maría esther solabarrieta que fue diputada de medio ambiente con josu bergara

quiénes formaban parte de la mesa de contratación los dos citados anteriormente y marta barco miembro de la diputación foral de bizkaia con josu bergara en el partido nacionalista vasco

etxebarria concejal de la misma corporación que javier ruiz moreno por el partido nacionalista vasco

miembro del ebb y miembro del tribunal nacional de justicia del partido nacionalista vasco pero es que no es un caso aislado

la del que fuera presidente de este parlamento que los atutxa dan para mucho

del que fuera también consejero del gobierno vasco han creado sociedades que se han llevado contratos millónarios de la administración pública empresas como ingeplan iaz ekin

puedo seguir hay muchas muchas empresas y todas siempre relacionadas entre relacionadas con el partido nacionalista vasco en todas ellas

en municipios gobernados por el partido nacionalista vasco o en instituciones controladas por el partido nacionalista vasco ingeplan y arkigest que aquí les sonará fue mencionada por el tribunal de cuentas en el caso de purines de carranza a nombre de esta última el hijo

facturó al municipio de bakio veintidós trabajos que fueron investigados por el juzgado

construcciones con adjudicaciones por más de cuarenta millónes de euros con administraciones públicas luego tenemos el pnv y las productoras

se ve que las productoras con las que mayoritariamente contrata son siempre las mismas y muchas de ellas han estado integradas por cargos del partido nacionalista vasco o son herederas de otras productoras de cargos del partido nacionalista vasco ejemplo prime time que nació de la unión de hiru koma e irusoin

a prime time se le adjudican de manera directa programas y da igual el resultado de audiencia de las mismas si falla pues se cancela la emisión de ese programa pero se le da otro se le adjudica inmediatamente otro o nos encontramos con productoras formadas por personas

vasca como por ejemplo baleko también tenemos asle seguridad

hizo pleno los cien puntos sacó en la adjudicación de dicho contrato lleva también la seguridad del metro de bilbao del que hablaré después y tiene numerosas adjudicaciones del gobierno vasco formando parte de él alguien que se le sonará también don iñaki alzaga etxeita

son innumerables este es el paisaje habitual de las contrataciones públicas de las instituciones en euskadi señor latxaga no le puedo dar el rosario porque tendría demasiadas letanías

en muchas instituciones vascas muchos empresarios si no son del partido nacionalista vasco no tienen oportunidades porque parece

presuntamente existir trato de favor en las adjudicaciones públicas siempre a determinadas empresas

siempre a un mismo partido el partido nacionalista vasco señorías ser del partido nacionalista vasco en una adjudicación da infinitamente más puntos que cualquier otro criterio y lo he dicho en otras ocasiones es que en muchos de esos empresarios me lo han dicho a mí

del partido nacionalista vasco no es una casualidad que siempre sean las mismas empresas vinculadas

familiares o afines a un partido las que se lleven las adjudicaciones no es casualidad que si uno hace un seguimiento de las contrataciones realizadas por las distintas instituciones también las del gobierno

siempre aparecen las mismas constructoras y si uno se va a ver el organigrama de esas constructoras siempre aparecen cargos afiliados o afines al partido nacionalista vasco

repasa las adjudicaciones de contratos para la prestación de servicios culturales o sociales también aparecen siempre sociedades vinculadas con el partido nacionalista vasco no es casualidad que si uno repasa los despachos que se encargan de prestar los servicios jurídicos a las instituciones gobernadas por el partido nacionalista vasco aparezca siempre

con el partido nacionalista vasco los mismos están siempre en muchas de esas empresas en muchos de esos despachos

que resultan adjudicatarias de los contratos y en los que la afiliación al partido nacionalista vasco es la nota característica y es como decía antes lo que más puntos

y esto no es casualidad esto es clientelismo señor latxaga esto es clientelismo

nos dio toda una tesis doctoral del clientelismo antropológico sociológico politológico histórico jurídico llámelo como le dé la gana es clientelismos y usted sabe perfectamente y en eso en euskadi tenemos mucha ventaja mucha ventaja cuando hace tres años interpelé

nos quería despistar sobre lo que era clientelismo y usted ha intentado hacer lo mismo pero creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo y es que ser del partido nacionalista vasco es tener una posición privilegiada y eso no siendo normal siendo grave no es lo más grave lo más grave es que cuando uno denuncia esto pues se encuentra con que es que ustedes encuentran que es lo normal que es lo normal

es que es esa su filosofía es que lo grave es que su filosofía es esa pues quién se va a llevar el contrato pues pues quién se lo va a llevar pues el del partido

que ustedes piensan de la misma manera que piensan que existe un derecho natural en este país a que solamente puede gobernar el partido nacionalista vasco porque vamos le recuerdo

parecía que habíamos contravenido las leyes divinas cómo puede haber un lehendakari en euskadi que no es del pnv

bueno pues lo mismo de la misma manera que ustedes consideran que existe un derecho natural a que el lehendakari siempre sea del partido nacionalista vasco existe un derecho natural a que las adjudicaciones de los contratos se las tiene que llevar el del partido el del partido guía

el del partido nacionalista vasco es que vamos más allá del clientelismo porque esto es ustedes piensan que es que es lo normal

porque claro en las mesas de contratación siempre parece haber una mano divina que dirige el pesebre de la contratación pública siempre al mismo sitio siempre a las mismas empresas en las que curiosamente no hace falta una investigación tan profusa

y empiece a ver cuál es la formación del consejo de administración

y una luego lo compara con las listas del partido nacionalista vasco oiga a veces

miméticamente se superpone y luego ya lo del entramado de las uno está en una empresa y a su vez esa empresa está en otra

del mismo y todas vinculadas al mismo partido nosotros no presentamos enmienda a la iniciativa de podemos porque estamos de acuerdo porque sí consideramos que en euskadi es necesario que se analicen los casos de clientelismo y corrupción y ya le digo no es tan complicado eso sí yo no sé si con nueve meses va a ser suficiente eso sí se lo digo porque es que hay tantos que claro

en el boletín oficial tira del hilo va al otro

es la única duda que pongo en esta iniciativa porque no sé

necesario que es necesario poner los medios que es necesario acabar con el clientelismo

ya le digo patente y que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo lo conoce y es que no hay más que salir a la calle para que te lo digan y es necesario

y sobre todo con la igualdad de oportunidades porque en euskadi hoy todos todos los que no son del partido nacionalista vasco quiero decir

medidas iniciativas concretas en las que venimos proponiendo para evitar entre otras cosas que se generen

redes clientelares puertas giratorias y por supuesto otros modos de corrupción

por sus consecuencias penales y por su consiguiente impacto mediático y hoy elkarrekin podemos trae una iniciativa que nos

sobre las redes clientelares y si abordamos este debate aunque sea de manera muy breve desde un punto de vista más científico se puede determinar sin lugar a dudas que en el sistema partidista actual existen dichas redes clientelares y no es un fenómeno nuevo ya que

estudiando desde el ámbito científico social es un fenómeno socio político que ha sido estudiado al menos durante las seis últimas décadas por científicos sociales como decía de diversas disciplinas y esto de alguna manera

multidisciplinaria e interdisciplinar del tema y de algún modo esto

podemos ha traído hoy al parlamento vasco donde de manera un poco desordenada todo hay que decirlo habla sobre empleo habla sobre fiscalidad habla sobre competitividad económica habla sobre igualdad de oportunidades y habla sobre la calidad

y comento esto porque me parece importante remarcar la complejidad de la cuestión por la de ámbitos y la de disciplinas que subyacen y por ende lo que supone

un estudio y elaborar un estudio sobre estas cuestiones desde el ámbito de la docencia universitaria y que vaya más allá de lo publicado y existente

y que vaya más allá de lo que es un plano meramente teórico nos parece como decía una iniciativa interesante pero

elaborada nos parece poco seria en su contenido más orientada a la búsqueda de una foto

para acabar con las redes clientelares y en ese sentido nos da un poco pena que hoy no se vaya a aprobar aquí una iniciativa que pudiera ser efectiva porque cómo operan cómo se organizan cuáles son las formas más habituales los sectores las vías el volumen y la tipología etcétera

los datos que hoy nos ha expuesto aquí la señora llanos hay infinidad de bibliografía

estudiado por cierto bastantes de ellos relacionados con la universidad

y por otro más recursos y ustedes hoy no hablan en su propuesta de nada de eso de nada de eso

los dos partidos con responsabilidades de gobierno en las principales instituciones de la comunidad autónoma vasca en aquellas más dinero se mueve más licitaciones hay y más contratos se firman vienen hoy aquí a confirmar a admitir están ustedes confirmando y admitiendo que hay redes clientelares que operan en la actualidad en araba

y como decía en euskera los abogados del gobierno vasco y de la diputación foral de bizkaia lo han ratificado con la acusación

a miembros con responsabilidades en el partido nacionalista vasco en aquellos años les acusan de ser responsables directos de delitos de malversación

y dice el propio gobierno vasco que queda acreditado el uso indebido para intereses ilegítimos y contra el interés público estamos señoras y señores ante una trama estamos señoras y señores ante una red y por eso décimos una y otra vez

porque el caso de miguel parte de una acusación particular no parte no parte de una acción

ni ha habido hasta la fecha voluntad política suficiente ni una actitud firme y contundente para acabar con ciertas prácticas corruptas y por eso

efectivas que recojan medidas y contemplen recursos vamos a seguir trabajando

tengo que felicitarle por el rigor de su discurso porque como era de esperar no ha dicho usted nada pero veo que tiende a bildu la mano como nuevo socio también en esto del clientelismo y ya debatiremos sobre el observatorio si

a esta cámara y no solo la foto con una rueda de prensa hoy hablamos de un estudio señor estarrona usted podría haber enriquecido la propuesta y no ha enmendado hoy el pnv

a nuestra proposición no de ley con la que parece querer blanquear la negativa de aprobar la del pasado veintisiete de septiembre pero van tarde y esto

comprometer a aprobar a la mayor celeridad posible una ley que refuerce la transparencia que hace años que debía de estar vigente todo los grupos aquí presentes trabajan en la misma ponencia para sacar dicha ley señor latxaga

de los medios materiales y personales que se consideren oportunos para mejorar en el ejercicio de sus funciones y luchar contra el uso

de recursos públicos para fines privados continúe dotando señor latxaga ha escuchado usted a la fiscalía el señor otaola

de malversación pero sin embargo evita pedir pena de cárcel desde luego

cuando te pillan el señor otaola menciona al presidente de la segundo república el señor manuel azaña para hablar de los funcionarios pero no se hace idea de la opinión que tendría el señor azaña

yo les animo a apoyar la iniciativa que ha presentado unidos podemos en el congreso de los diputados para la creación de una fiscalía anticorrupción en euskadi

del país vasco ya declaró la necesidad de que euskadi contará con una fiscalía tal desconozco la causa por la cual hoy veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho aún no se ha creado dicha fiscalía cuando comunidades autónomas como cataluña madrid baleares andalucía murcia canarias o país valenciano

se ha demostrado además que cuando existe una fiscalía anticorrupción es decir cuando se tiene de verdad más medios materiales y humanos para detectar juzgar y castigar los casos de clientelismo y de corrupción en general es cuando más

no existen unos territorios que sean esencialmente corruptos y otros no no es posible diagnosticar únicamente a través del número de procedimientos penales en curso

el nivel de corrupción real una cuestión vital como son los recursos para combatir

de recursos públicos que supone el clientelismo no puede estar en manos de la decisión y el criterio individual de una persona sino que debe asegurarse por ley por eso

a su grupo a que vote y también a eh bildu a favor de esta iniciativa en el congreso de los diputados y mientras tanto en este parlamento

realicemos un estudio que nos dé pista de la lacra que supone para la sociedad vasca

por un partido que ha hecho de su capa un sayo con las instituciones que son de todos y de todas señor latxaga mila esker eskerrik asko macazaga andrea

en mi primera intervención que todos estos casos de los que hoy trae causa esta iniciativa

tomó la decisión política de hacerlo y están ahí por ese motivo y no por ninguno más por lo tanto tampoco voy a permitir acusaciones veladas del señor estarrona

no por actuaciones de nadie más y lo que hemos querido hacer con la enmienda es tratar de alcanzar los máximos acuerdos posibles yo entiendo que cada cual quiera apuntarse aquí un tanto

ratificar los acuerdos cuando son de amplio espectro y por eso

no solo como forma de enriquecimiento ilícito sino por el uso del poder público

y apostamos por un trabajo serio en la ponencia en la que como decía la señora macazaga estamos todos que trate de que la ley establezca las mejores garantías

y que consoliden prácticas de auténtica transparencia como las que empezaron

y una apelación que me parece importante al conjunto de las instituciones a todas para que colaboren ante cualquier denuncia o cualquier sospecha de mal uso de dinero público no voy a negar que hemos estado intentando hacer un acuerdo de enmienda de transacción con los proponentes y que sinceramente nos hemos encontrado con una postura que a nosotros nos parece de cierta intransigencia de no admitir que se vote por puntos yo puedo entender los argumentos de la señora macazaga para no aceptarlo pero es verdad

como para aceptar la votación por puntos porque en esa votación cada partido establece sus matices y también se retrata pero se permite por lo menos alcanzar

pero evidentemente nosotros seguiremos apostando por la enmienda que hemos presentado eskerrik asko pastor jauna

que dan por iniciada la campaña electoral y estoy seguro como ha dicho creo que el señor pastor de que veremos multitud de iniciativas

pero no solo una campaña electoral sino también una campaña de difamación

de su grupo político le va a tocar y le está tocando últimamente se la porta coz de ese grupo político

negociación de una transacción o su intransigencia a la hora de poder votar por puntos de alguna forma yo creo que es algo que le retrata y que pone en evidencia cuáles eran sus intenciones desde el principio sus intenciones no eran sacar adelante esta iniciativa

en todo o en parte si no simplemente dejar en una esquina marginar al partido nacionalista vasco esa era su intención verdadera y no

no la de alguna manera hacer ese estudio ese estudio que efectivamente nueve meses va a ser poco sobre todo si hay que incidir un poco

que ver con la competitividad la recaudación fiscal el empleo la igualdad de oportunidades

visto lo visto que ese estudio va a promover medidas para la erradicación de esas prácticas que según se ha dicho el señor estarrona vienen de la edad

yo tendría interés si saliese esta iniciativa en ver sus conclusiones realmente

que son la mayor de las mentiras con respecto al trabajo

yo sé de primera mano quien trabaja para sacarla adelante y no voy a decir más se quien trabaja para sacarla adelante y quién no de acuerdo y los acuerdos a los que hacía usted referencia que nosotros nos hemos negado a votar algunas cuestiones algunas cuestiones

que en aquella ocasión en el pleno de septiembre al que hacía referencia se

se hizo como usted quiere hacer ahora que hay que votar el conjunto de la iniciativa y no se pudo votar por puntos nosotros no tenemos ningún problema no tenemos ningún problema a la hora de decir lo que hemos dicho en esta tribuna yo no iba a dirigirme a la señora llanos pero lo voy a hacer

para poder hablar de un tema como el que tratamos hoy aquí y ustedes no lo están permítame un consejo el rencor

y menos para la cosa pública me parece que la señora llanos de alguna forma también ha citado una letanía

ha vuelto a recitar y no ha hablado para nada no ha hablado para nada de lo que estamos votando hoy aquí del dichoso estudio del famoso estudio usted se ha limitado a recitar una serie de cuestiones que si el consejo de administración

pero no se ha dedicado a ilustrarnos el fondo de la cuestión y con respecto a lo que se va a votar señora llanos quieren promover de verdad ustedes un estudio de la upv sobre redes clientelares en euskadi

porque la medida puede causar furor y hacer que podemos promueva

y a ver que van a decir ustedes señores y señoras parlamentarios hemos de trabajar todas y todos

con rigor y responsabilidad sin intentar obtener rentabilidad política de supuestas irregularidades ahora bien no dudaremos

toda estrategia de difamación que se haya producido y que de paso desprestigia a nuestras instituciones protagonizando algún que otro numerito

que represento en definitiva señorías un sí rotundo a una ley que refuerce la transparencia de la actividad pública

un sí rotundo también a medidas efectivas efectivas señora macazaga que refuercen el control de la actuación pública en las administraciones

gracias de nuevo señora presidenta bien la verdad es que lo que no hubiera pensado es que me iba a tener que dirigir a bildu en este punto señor estarrona parece mentira nunca hubiera creído tampoco lo que voy a decir echo de menos al señor lópez de munain

bastante pero que en este tema porque yo ya no sé por lo que usted ha explicado usted aquí que también nos ha dado una visión histórica

y una visión histórica se ha retrotraído a los romanos nada menos pero yo no sé por lo que parece usted va a votar en contra yo no sé si dentro de los acuerdos de país está también el mirar hacia otro lado

entre todos pero la verdad es que es algo sorprendente

y por lo menos con respecto a mí no sé por qué dice lo del tema electoral porque lo mismo que he dicho hoy aquí muy parecido lo dije en noviembre del dos mil quince que no sé qué rencor que podía tener en ese momento y que no sé qué elecciones había pero vamos muy parecido muy parecido y usted no es quién para repartir legitimidades

se habla ustedes tampoco la tienen o qué pasa que el caso de miguel como ha sido aquí

que la había mandado fotocopiar los casos aislados de corrupción del pnv oiga dos hojas enteras y venga y venga

de clientelismo en mi intervención de corrupción y ustedes lo que quieren hacer ver es que aquí hay una arcadia feliz y que aquí no hay corrupción

pero corrupción aquí también y corrupción aquí suya suya

que del partido popular no tenemos legitimidad para hablar de estos temas porque entonces en los siguientes temas que se traigan de este tema ustedes tampoco pueden salir ustedes tampoco

es que el glosario es que si empiezo es que acabo los cinco minutos no los quince enteros diciendo empresas los quince enteros

loizate landaburu etxea y no sigo porque es que no me da tiempo que no me da

estoy hablando de clientelismo siempre los mismos y siempre del mismo partido

claro que quiero que es complicado ya ya le digo que es complicado que se puede hacer ya le digo también que se puede hacer nosotros con un ordenador mi compañero

una mina claro las conclusiones ya a ustedes

no me he dedicado a hablar del estudio oiga me he dedicado a hablar por qué está justificado que se haga un estudio y usted todo lo lleva a la ley de transparencia que me parece muy bien de verdad me parece muy bien

porque si estuvieran ustedes solos la ley de transparencia que podría salir sería como la de su comisión ética un juan palomo yo me lo guiso y yo me lo como o sea menos mal que no están ustedes solos

porque si no ya le digo como su comisión ética juan palomo total claro que es necesario

si en un pantallazo se pudiera poner en ese ejercicio de transparencia las empresas adjudicatarias de todas las instituciones de euskadi

en un pantallazo que usted ponga empresa no se qué

todos los bueno solo con eso solo con eso se vería quién trabaja en este país a quién se le adjudican las obras en este país quién se lleva los contratos pero los de construcciones los sociales

los servicios jurídicos lo de los servicios jurídicos se lo digo por experiencia

de una cosa que sucedió en la diputación foral de bizkaia los mismos

es que esto no es un pulpo es que esto es

y en el clientelismo se lo he dicho antes somos los campeones pero el clientelismo vasco además tiene una idiosincrasia propia como todo lo que hacemos aquí

y es que en otros sitios se oculta pero aquí

uno lo dice sin sonrojarse porque como le he dicho antes lo peor en euskadi es que a ustedes les parece normal que el clientelismo exista a ustedes les parece normal que los únicos que trabajen que los únicos que se lleven las adjudicaciones sean quiénes van a ser los del partido muchas gracias

no se preocupe euskal herria bildu nunca ha recogido nueces

diputaciones ayuntamientos mancomunidades etcétera y euskal herria bildu es garantía de corrupción cero cero por lo tanto no se preocupe tanto porque podamos ir a recoger nueces de nogales que puedan estar podridos de todas maneras y esto ya entra un poco en el ámbito de lo personal les voy a contar que con cuatro años me acuerdo mi amona

y planté aquí en la calle enrique eguren de vitoria gasteiz planté una nuez en una maceta y hoy ese nogal treinta y cuatro años después está en el pueblo de etxabarri ibiña dando unas nueces estupendas

y si usted quiere cualquier día de estos me paso por su sede

he dicho en mi intervención que el mes que viene traeremos la propuesta de ley para la creación de la oficina de

buenas prácticas y contra la corrupción la propuesta de ley

el mes que viene la traeremos para su tramitación pero hay otra serie de iniciativas que están en marcha o que por lo menos

sobre el tribunal vasco de cuentas públicas que ustedes no están haciendo nada junto con el partido popular para que esta esté en marcha

y ustedes mediante la no tramitación y puesta en marcha de esta ley han permitido

entre otras cosas señora macazaga han permitido que el presidente del tribunal vasco de cuentas públicas el señor

por él mismo dicho haya sido renovado para seguir presidiendo dicho tribunal en los próximos años

ustedes dos para la señora llanos y macazaga escuchar atentamente

antes de sacar conclusiones precipitadas porque nosotros y nosotras lo que hemos dicho es que nos da pena

que hoy no se vaya a aprobar aquí una iniciativa que pudiera efectiva pero euskal herria bildu va a votar a favor de esta iniciativa aun sabiendo que su efectividad va a ser muy limitada porque todo lo que tenga que ver todo lo que venga a esclarecer

en esta parte de nuestro país todo será bienvenido eskerrik asko estarrona jauna

otra vez de nuevo pedimos a esta cámara un pronunciamiento sobre la línea cuatro del metro de bilbao y creemos

que en otras ocasiones es verdad que ya lo hemos solicitado

llegamos a un acuerdo en esta cámara por unanimidad pero ante la respuesta que a nuestra interpelación nos dio la señora tapia la señora consejera

todavía que entonces aunque pues la verdad es que parece que los acuerdos

el gobierno vasco no tiene a bien tenerlos en cuenta

y además cuando ese acuerdo se tomó en abril algunos jugaban con las cartas marcadas

el doce de abril de dos mil dieciocho esta cámara llegó por unanimidad a un acuerdo un acuerdo bien claro bien corto en el que se instaba al gobierno vasco y al consorcio de transporte de bizkaia a formular para el año dos mil dieciocho el estudio informativo

ferrocarril metropolitano de bilbao tramo moyua rekalde garantizando un proceso participativo y recoger en el año

para la elaboración de un proyecto constructivo de este mismo tramo pero ello no se ha cumplido es más

que lo apoyan en concreto al partido nacionalista vasco porque aquí no se apoyan las iniciativas sin el visto bueno del gobierno eso está claro

falso porque a la vez que daban ese visto bueno estaban realizando trámites en sentido contrario al visto bueno

del ptp de bilbao metropolitano concretamente en la página cincuenta y tres de la memoria dice lo siguiente continuar con el desarrollo previsto de la red metro bilbao con la construcción de la línea cuatro del metro rekalde matiko y línea cinco etxebarri hospital pues bien en julio de dos mil dieciocho

metro bilbao no debe aparecer en el futuro ptp de bilbao metropolitano que se está elaborando puesto que no tiene referencia en las conclusiones de los pts ferroviarios vigentes de bilbao y bilbao metropolitano

dice que para que apareciera la línea cuatro del metro debería haber un acuerdo institucional y que debiera

por lo que él la traslada no lo está sino que lo que está definido es la opción del anillo tranviario

y que ahí se incluirá la valoración de las necesidades de rekalde e irala esta carta es de julio de dos mil dieciocho y este es el estudio un estudio que deja aparcado

la consejera tanto en la presentación de los presupuestos como en la contestación a la interpelación que a mí me dio y yo les pregunto señorías qué es un acuerdo institucional

pues a tenor de la comunicación del gobierno vasco aparece confirmado que los acuerdos que se adoptan por unanimidad

no tienen ningún valor para ello porque consideran que no hay acuerdo institucional qué es acuerdo institucional señores del partido nacionalista vasco lo que se decida en este parlamento

por los representantes de los ciudadanos vascos eso no es para ustedes un acuerdo institucional no vale para nada aunque ese acuerdo se apruebe por unanimidad no hay acuerdo institucional señores del partido nacionalista vasco aunque ustedes lo voten

eran conscientes de que

el acuerdo al que nosotros llegáramos y yo me pregunto qué fue lo que sucedió

a ustedes también les engañaron o fueron ustedes los que nos engañaron a todos los demás para no perder la votación pero ustedes también eran conscientes de que el gobierno vasco no tenía ninguna intención de tener en cuenta el acuerdo aquí adoptado a ustedes también les dijeron como en un pasillo se les dijo a alguien en juntas generales de bizkaia que voten lo que quieran que aquí no se va a hacer nada a ustedes también se lo dijeron

vino a decir la señora consejera el otro día cuando contesto a nuestra interpelación no se va a hacer el metro esa es su palabra señores del partido nacionalista vasco están demostrando que no tienen palabra que la palabra de vasco ustedes no la pueden utilizar porque no son de fiar

porque diez años después siguen sin cumplir lo que prometieron

si hoy eso no vale nada pues hombre lo que aprobamos en marzo pues una se pregunta claro qué valor va a tener pues menos todavía para ustedes menos todavía

antes que como digo fue remitida por el director de infraestructuras y transporte del gobierno vasco

no debía aparecer en el futuro ptp de bilbao y como digo hablaba de ese estudio informativo un estudio

como que era intentó colar que era el que aquí se había acordado pues no en absoluto

ella sabe que no lo es y todos sabemos que no lo es que el estudio que ella anunció en los presupuestos y con el que me contestó a mí en la interpelación nada tiene que ver con el estudio que acordamos aquí en marzo y que volvemos a solicitar

porque lo se acordó entonces y volvemos a solicitar es un estudio informativo del tramo moyua rekalde de la línea cuatro metro bilbao eso es lo que acordamos en marzo

no sé si engañados o intentándonos engañar a nosotros pero desde luego sabiendo

que no tenía ninguna intención el gobierno vasco ni de hacerlo ni de cumplirlo porque lo que está claro es que se pretenden que la línea cuatro no aparezca en el ptp de bilbao metropolitano pues la intención

y nosotros aquí traemos esta iniciativa para evitarlo para poner nuestro granito de arena para que el metro sí llegue a rekalde para que el metro llegue al resto de los barrios de bilbao

porque se lo merecen porque creemos que se lo merecen porque no son vecinos de segunda

esperando porque como dicen no es un capricho es una necesidad

de esos barrios no se merecen más promesas se merecen certezas porque como dice la interpelación bilbao es la capital vasca con más desigualdades sociales

la diferencia de renta entre los distintos barrios es notoria la media en bilbao son veinte mil trescientos euros pero mientras que en abando e indautxu la renta llega

en los barrios sur de bilbao como por ejemplo iturrigorri peñascal es el último

también tienen menos equipamientos y peor transporte público

las deficiencias del transporte la dificultad para conectarse con el resto de bilbao y con el resto de bizkaia además de la movilidad de los vecinos hace que el barrio sea poco atractivo para los posibles negocios que pudieran instalarse los vecinos han recogido firmas

el pasado sábado y están anunciando nuevas convocatorias nuevas convocatorias para que lo prometido hace diez años diez años

pero no le importa no le importa que lo hayan prometido y no le importa dejar todas esas promesas y todos esos proyectos en papel mojado y vuelvo a decir lo que dicen los vecinos no es

es una necesidad porque tienen razón en sus reivindicaciones porque es normal que se pregunten qué pasa que los vecinos de bilbao no son todos iguales no tienen derecho a tener los mismos servicios porque yo que vivo en indautxu tengo no una sino dos paradas de metro a dos minutos de mi casa y un vecino de

porque tiene que hacer una peregrinación si quiere ir a cualquier otro punto de bilbao

una peregrinación se habla de la responsabilidad en el gasto de dinero público

por qué es responsable que llegue a moyua y a irala no por qué es responsable que por el casco viejo pase el tranvía el autobús el metro y euskotren

y hay que estudiar las duplicidades y puestos en esta tesitura por qué es responsable que el metro llegue

porque quiero hacer un apunte en relación a la línea cinco porque los vecinos de galdacano también han anunciado una manifestación para este sábado porque también se sienten engañados se sienten vecinos no se ya si de segunda o de tercera

que les da igual los acuerdos los compromisos les de igual los ciudadanos y ustedes aquí salen

y se les llena la boca hablando de incumplimientos eso sí de los incumplimientos de otros claro porque cómo le llaman ustedes a que el gobierno vasco prometiera hace diez años una línea de metro que iba a llegar a rekalde y estemos peor que en el punto de partida

sorpréndame a ver qué término lingüístico utiliza cómo le llaman ustedes a que votar una cosa en marzo que ese acuerdo

que quede en papel mojado y que ahora proyecten algo radicalmente distinto eso no es un incumplimiento

porqué cuando son otras las instituciones como por ejemplo en su momento el gobierno de españa tenía dificultades presupuestarias

presupuestarias y si se hablaba de la responsabilidad en la utilización de los fondos públicos entonces se contestaba por parte de ustedes que es que no hay compromiso con euskadi

no hay compromiso con euskadi entonces aplicando su razonamiento señores del partido nacionalista vasco qué tenemos que deducir

con rekalde con irala con san adrián con los barrios del sur de bilbao

son nacionalistas antes que responsables políticos y todos a una como fuenteovejuna porque el señor rementeria ayer lo demostró claramente

antes que diputado general que si el partido le dice

vamos él se olvida como un solo hombre el primero nada

si eso ya el transporte en bizkaia a donde no llega ahora ya se hace un estudio verdad para ver qué es más rentable

los recursos públicos para ver cómo se es responsable eso sí siempre con determinados barrios o con determinados municipios

del partido y cómo le llamamos a eso

qué décimos que es coherencia coherencia porque la verdad es que eso sí al señor rementeria hay que reconocerle que tiene coherencia porque cuando este punto se llevó a las juntas generales de bizkaia él no lo votó con lo cual él no puede decir

no sé qué le pasó exactamente que no pudo entrar a la votación y ese punto no lo votó

no sé si llamarle coherencia por lo menos consigo mismo es coherente desde luego con los

la coherencia brilla por su ausencia el compromiso por su ausencia eso sí el metro

que parece el aeropuerto de castellón como me lo va a sacar usted ya se lo voy sacando yo eso sí que es un aeropuerto de castellón

sino no entra nunca nunca eso sí era vital vital y se enterró dinero allí no le digo cuánto

el que teníamos en bilbao se nos quedaba pequeño que somos de bilbao

y había que hacer uno más grande vacío

la bienal de máquina herramienta y pocas cosas más se llenaba antes cuando

la mayor parte del año vacío y también costó

también costó pero eso la súpersur

es una utilización eficiente de los recursos públicos y responsable que el metro llegue a rekalde no no

mire yo creo que ya va siendo hora ya va siendo hora

están esperando alguna vez vean no ya que se termina por lo menos
que se empieza nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

berriro ere gure aldetik esatera proiektu honen alde gaudela venimos a ratificar el acuerdo unánime que se logró en esta cámara

fue perfectamente justo medido y que viene a colación de lo que desde el minuto uno ha venido defendiendo

de los socialistas vascos en esta cámara un acuerdo que era claro en tres términos primero

punto segundo poner en marcha un proceso participativo y tercero que hubiera una consignación presupuestaria en los presupuestos en el proyecto de presupuesto de este año para

yo creo que era claro y en este sentido el partido socialista no se ha movido ni medio milímetro y hoy volvemos a ratificarnos como decía en ese acuerdo que alcanzamos de manera unánime por parte de todos los grupos parlamentarios el pasado doce y nosotros creemos en este proyecto no hoy sino desde el minuto uno desde el minuto cero cuando fuimos nosotros

quienes iniciamos este proyecto quienes

las bases de este proyecto durante aquella legislatura un proyecto que hay que creérselo como decía nosotros nos lo creemos y que durante todo este proceso durante todos estos años siempre ha contado con el respaldo de los socialistas en todas las instituciones no solo en este parlamento en el gobierno vasco

de bilbao por qué porque creemos que tenemos múltiples razones que merecen la pena que este proyecto sea una realidad que merece la pena que los socialistas

que uniría moyua con rekalde cohesiona a los barrios de bilbao es una buena oportunidad para conectar el barrio de rekalde

de bilbao porque además va a permitir que esos vecinos cuenten también con una conexión con otros medios de transporte con otras líneas de renfe

con líneas de otro tipo de transporte público como puede ser el autobús por tanto es una conexión de esos barrios con el centro de bilbao de ese barrio con el resto de los barrios de bilbao pero también con el resto de bizkaia también con el resto euskadi segundo porque entendemos que es una apuesta clara por el transporte público en este país porque entendemos que es una apuesta clara por el transporte público en detrimento

privado porque es una apuesta también por un transporte público eficiente y sostenible que va a permitir mejorar frecuencias que va a permitir acortar los tiempos de los trayectos desde ese barrio o de esos barrios de bilbao hacia otros puntos de la ciudad

porque también favorece el desarrollo económico de los barrios en la medida de que se conecta a estos barrios con el resto de bilbao de manera mucho más eficiente por tanto también es una oportunidad para el desarrollo económico de esa

cuarto porque permite también acometer proyectos de desarrollo económico en base al desarrollo de esta línea de metro que va a permitir también acometer proyectos de mejora urbanística que va a mejorar la calidad de vida

y quinto lo que es más importante que responde a una reivindicación histórica

entendemos que es una buena oportunidad para impulsar los barrios de bilbao y concretamente el barrio de rekalde irala

los socialistas vamos a estar ahí no nos hemos movido nunca de esos parámetros no nos hemos movido nunca de esa apuesta y hoy como decía volvemos a ratificarlo aquí al igual que lo hemos ratificado recientemente en las juntas generales de bizkaia

en el ayuntamiento de bilbao por eso venimos hoy aquí

mantenemos nuestro compromiso mantenemos nuestra palabra dada y entendemos que hoy una vez más volvemos a tener una buena oportunidad para que de manera unánime

nos trae a esta cámara para su debate la línea cuatro del metro de bilbao

cuyo objeto era conocer si se había dado y cómo se había dado el cumplimiento por parte del gobierno al acuerdo adoptado por unanimidad en esta cámara

a este respecto el treinta de octubre tuvo entrada en el registro de este parlamento

en ese informe se decía sobre dicho acuerdo lo siguiente en la actualidad se encuentran en fase de redacción los pliegos del nuevo estudio informativo de la línea cuatro del

dentro de los cuales se establece un periodo para garantizar la participación ciudadana y la forma de articular la misma dentro del estudio

se encuentran en redacción los estudios relativos a la planificación estratégica

por otro lado el pasado día siete de noviembre la consejera de desarrollo económico e infraestructuras presentó en esta cámara el proyecto de presupuestos para el dos mil diecinueve de dicho departamento donde explicó que para el dos mil diecinueve había un estudio informativo de transporte público en rekalde irala y toda la zona sur de bilbao ele cuatro por importe de mil cincuenta millónes de euros y después se acometerá el proyecto constructivo correspondiente en base a la misma partida es decir

se lo recordase usted señora llanos y en la interpelación sustanciada el nueve de noviembre le dio cumplida respuesta sobre el estado del tema

a preguntas escritas y orales de otros grupos parlamentarios con ello a nuestro juicio se daba por respondida la cuestión planteada

la moción a debate y sobre ella hablaremos nuevamente decía un parlamentario

en esta misma cámara que cualquier responsable político de este país tiene que ser claro en el sentido de no prometer lo que no puede cumplir y honesto para decir la verdad aunque no guste

y actuar con seriedad y rigor y hoy añadiría algo más alguna virtud más como son la lealtad y el respeto a los compromisos firmados y adquiridos y nosotros podemos decir con la cabeza bien alta que nuestros representantes políticos así lo han hecho tanto en legislaturas pasadas como en la anterior cuando se afirmó que los esfuerzos inversores

que por cierto usted también demandaba señora llanos y en la presente legislatura no sé si todos podrán decir lo mismo allá cada uno con su conciencia y responsabilidad

en las capitales y su entorno de influencia no le voy a repetir las actuaciones llevadas a cabo desde el dieciocho de diciembre que ya se han puesto en manifiesto en varias ocasiones el programa de gobierno de la presente legislatura dice expresamente continuar

por tanto nosotros entendemos que los compromisos adquiridos por el gobierno se están llevando a cabo hay un proyecto constructivo que se está realizando el tramo moyua matiko

en el que se producen variaciones sustanciales por el cambio de la planificación de la obra de la estación de moyua que obligan a tener que realizar un nuevo estudio informativo reelaborarlo y surgen nuevas situaciones que pueden convertirse en oportunidades de mejora y en este sentido respaldamos la actitud ambiciosa del departamento de desarrollo económico e infraestructuras de querer darle un alcance mayor a dicho estudio y de ahí nuestra enmienda de totalidad ampliando el alcance del estudio informativo de la línea cuatro

teniendo en cuenta las líneas ferroviarias ya existentes para poder optimizar en su caso las mismas en la definición

hay algunas situaciones que han variado desde el pasado mes de abril y que justifican nuestra enmienda de totalidad y aunque las explicó la consejera

es necesario repetirlas el veinticuatro de octubre se firmó con el ministro de fomento

a bilbao a abando entonces quedó despejada la incógnita del cómo y el cuándo

entre abando y santurtzi que da servicio a la margen izquierda existe

que discurre en el entorno de rekalde irala que el pasado lunes ha sido transferida a esta comunidad y también está la permanente reivindicación de la trasferencia de la línea balmaseda bilbao que exige estudiar qué servicio

elaborado por el ayuntamiento de bilbao y cuyas medidas fueron presentadas en junio de este año como dijo la señora consejera se va a hacer un estudio informativo del mejor transporte público ferroviario posible

de bilbao y para que no haya dudas dijo con condiciones y calidad de metro independientemente del color con el que se preste el servicio que tenga calidad de servicio y frecuencia suficiente son

por lo tanto es evidente que el gobierno en ningún caso ha descartado la línea cuatro sino que está abierto

estudiando los costes y escenarios en que pueda moverse la inversión y trasladando dichas alternativas al ámbito de discusión institucional y de participación pública con una visión integral

para rekalde para irala para los barrios del sur incluyendo zorroza y basurto en definitiva la mejor solución para bilbao entendemos que tratándose de temas de movilidad el no moverse ni un ápice no parece que sea una virtud para destacar

decía usted que nosotros hemos prometido dígame en qué programa electoral en el segundo turno del pnv o en qué acuerdo de gobierno formado por el pnv se menciona esa promesa tal y como usted lo dice

electoral en materia de infraestructura sí que dice también con una cuidadosa terminología que abordaremos una apuesta cierta dice por las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao aunque también dice en el mismo apartado de infraestructuras

y que revisarán bajo criterios de eficacia presupuestaria las obras que estén en fase de diseño esa es su coherencia también a la que hacía mención

el pasado doce de abril nos presentan una moción en la cual

sin tener el estudio informativo es decir malas consejeras las

plantea declarar la línea cuatro infraestructura prioritaria acelerando su construcción prioritaria qué tiene entendemos prioritaria lo dice el diccionario que tiene prioridad o preferencia respecto a otra señora llanos puestos a hacer demagogia que parece que es lo que les gusta para usted qué es más prioritaria la finalización y puesta en funcionamiento del tren de alta velocidad

qué es más prioritaria la línea cuatro o la línea cinco como decía usted hay muchas infraestructuras a las que está trabajando este departamento por tanto entendemos que

línea cuatro metro bilbao le aparecerá esta carta es decir que no es ninguna carta secreta

lo que dice es que no se puede hacer así dice toda nueva propuesta solución definida

u otros debe ser consensuado entre las diferentes instituciones y claro esto

yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir a los instrumentos de planeamiento en vigor para plantear una infraestructura y los instrumentos en vigor no son de ayer ni de antes de ayer son el pts de dos mil tres bilbao metropolitano y el ptp

que dicen lo que dicen por lo tanto mírese antes de afirmar qué son

para eso para eso se necesita el estudio informativo que estudie todas las alternativas

nuestra apuesta ya lo hemos dicho reiteradamente es por la integración de los sistemas de transporte buscando que los recursos económicos materiales y humanos destinados al transporte sean eficientes y para ello es necesaria una planificación integral del mismo y ver las ver las disponibilidades económicas y presupuestarias y esta planificación integral como se comentó en el pleno anterior

se ha de hacer en la autoridad de la movilidad de bizkaia que es el que está realizando la reflexión estratégica con esa visión integral e integradora

compartimos las palabras que ayer pronunció el diputado general de bizkaia en el sentido de que tenemos que priorizar dar el mejor servicio posible en calidad y en tiempos de frecuencia adecuados también lo dijo la sailburu

todo ello de la forma en que se viene trabajando desde hace muchos años y que tiene sus reconocimiento recientemente señora llanos a principio de este mes de noviembre

dice que bilbao cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte público del estado español entre veintiuno ciudades analizadas reciben las máximas puntuaciones el tranvía el metro y los autobuses analizando parámetros como la puntualidad

no es consecuencia de la inercia a la que se refería el señor alonso el pasado viernes señora llanos

y debemos prestar a los vecinos y vecinas de rekalde irala
y la zona sur de bilbao besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

lo ha explicado la señora llanos ella vive en indautxu y tiene metro yo vivía en el casco viejo y tenía metro vivía en san ignacio

personas están sin no sin metro sin un transporte

de bilbao que no son caprichos son barrios de trabajadores y de trabajadoras que merecen

coger la barik y montarte en el metro y llegar en un tiempo determinado a tu lugar de trabajo no es un capricho

hicieron caer a la única alcaldesa franquista que dejó su cargo y harán que se haga el metro de bilbao le pese al pnv le pese a quien le pese

en la variante sur otros doscientos millónes o más doscientos millónes para una carretera que no necesitamos

con que se introduzca que no se introduzca en la revisión del ptp eso es lo que dice el mikel gurutzeaga zubillaga eso es lo que se dice gero

esan zuen que rekalde no tiene por qué necesitar soluciones no soterradas rekalde soluciones

que rekalde igual no necesita soluciones no soterradas cuando llevan décadas pidiendo que se elimine

y que limita la vida de los vecinos y vecinas de rekalde hay que tener jeta rostro y morro hay que tenerlo

y encima el único espacio natural que nos queda entero en bilbao encima nos lo van a poner con una mancha

como dicen mis hijos muerta me ha dejado muerta

las promesas y vender humo porque esta infraestructura nuestro grupo la lleva llevándola en sus programas electorales desde hace mucho tiempo lo que pasa es que

no hemos gobernado como para poderla hacer efectiva

dice usted que no se puede vender humo que hay que ser muy serio con los recursos públicos que hay que hacer un estudio vaya usted a rekalde y cuénteles todo eso vaya usted a rekalde y cuénteles todo eso porque eso sí que suena a vender

yo y otros grupos hemos estado con la plataforma que

esta línea cuatro en la que forman parte vecinos comerciantes plataforma que ha estado con todas las instituciones y a todas las instituciones a las que ha ido les ha dicho lo mismo que es la necesidad

que no era un estudio se amoldó el estudio de la plataforma

de la línea cuatro que es que le ha comprado el discurso al partido nacionalista vasco debe de ser que los acuerdos de país llevan a todo pero es que le ha copiado usted hasta la forma de hacer el discurso esa ambigüedad

es lo que hemos visto en su intervención para en definitiva no apoyar que es lo que va a hacer hoy aquí la línea cuatro del metro bilbao la línea

eso es lo que aprobamos en marzo

tramo moyua rekalde estudio informativo del tramo moyua rekalde

mire o sea no me venga usted sabe perfectamente lo que aprobamos nos han intentado hacer colar que ese estudio informativo del tramo moyua rekalde que viene al final creo luego se lo dirá igual el señor andueza que la tenía el estudio ese

que usted lo sabe perfectamente que usted sabe perfectamente que estábamos hablando del tramo moyua rekalde del estudio informativo y después del estudio informativo del proyecto constructivo hoy a usted le ha tocado hacer el publirreportaje porque como cree que tiene que llenar

el publirreportaje del cambio

moyua y de que vienen aquí otra vez que ahora ya como le ha dicho y es verdad el representante de podemos como llega a abando noticia vamos noticia nueva que llega el ave

como hemos sabido esto hay que cambiarlo usted me habla

la suya y habla de lealtad de los compromisos adquiridos

a sabiendas de que se va a hacer la contraria a sabiendas de que se va a hacer la contraria porque ustedes en marzo todos debatimos y todos acordamos ese tramo y ya usted habla de que ya bueno metro ya no ferrocarril como va por vías

ferrocarril y como dijo ayer el señor rementeria y para qué va a tener que estar soterrado para qué

vaya por debajo que el ferrocarril llámelo como le dé la gana vaya por debajo

los de rekalde si acaso ya tiene un tren que se conformen que el tren vaya

es que eso cuesta mucho dinero y usted habla de responsabilidad social

metro llegue a rekalde no es responsable socialmente y usted me habla a mí de mis programas electorales mire yo le digo que nosotros llevamos demandando esta línea es que me acuerdo de montar sabe usted lo que es el tren chu chu

campañas electorales saca un tren chu chu a la calle pues nosotros sacamos un tren chu chu para demandar

desde entonces estamos demandando esa línea y claro que decíamos administrar con eficacia y administrar con eficacia

o con el tren de alta velocidad que es lo que ustedes intentan hacer lo que ustedes intentan hacer es enfrentar a rekalde con galdakao

no llevan demasiado tiempo esperando bastante más tiempo que otras infraestructuras que se están planteando porque oiga que hable usted de prisas de verdad yo ya es que no sé debe de ser

las definiciones las ponen distintas porque yo llamarle prisa a diez años vamos en el concepto del castellanos que yo conozco no está pero vamos ya le digo que igual el partido nacionalista vasco tiene un

que no es serio usted sabe perfectamente lo que votó y me puede contar ahora

que lo que se acordó aquí en marzo que por eso es necesario volver a traerlo porque lo que se acordó aquí en marzo que es lo que quieren los vecinos que es lo razonable

es que la línea cuatro del metro no de un tren

no de un metro eso es lo que se garantiza a rekalde porque se lo merecen y porque una utilización responsable y eficaz de los recursos públicos

muy tranquila porque no nos hemos movido de nuestra posición en ningún momento nosotros seguimos defendiendo lo que hemos defendido siempre y tenemos la conciencia como decía tranquila somos de palabra somos coherentes con las gestiones que hemos venido

somos coherentes con lo que hemos defendido a través de nuestros programas electorales

y somos perfectamente coherentes con lo que establece el programa de gobierno por tanto seguimos defendiendo exactamente lo mismo y no tenemos ningún motivo para dejar de hacerlo hori ez da gure estiloa guk beti defendatzen dugu

gauzak los socialistas como decía mantenemos nuestra palabra dada somos responsables de lo que décimos y en este sentido yo hoy he venido a defender

cada cual que defienda la suya cada cual que se retrate en función de lo que hoy

hemos entendido que la extensión del metro de bilbao la extensión del transporte metropolitano de bilbao sea una

haciendo y lo seguimos defendiendo por tanto como el movimiento se demuestra andando somos partidarios de seguir avanzando hoy me ha venido a la memoria

lo que algún parlamentario defendió en esta misma el pasado doce de abril y lo voy a leer porque hago esas palabras mías no fui yo quien lo dije cada cual sabrá quién lo dijo

en los programas electorales de las últimas legislaturas y en el subsiguiente programa de gobierno aparece la línea cuatro por tanto

el que esto no sea una realidad pues es cierto yo lo defiendo

manteniendo otros no sé lo que harán yo respondo ante lo que hace mi grupo ante lo que defiende mi grupo y ante lo que vota mi grupo

lo que hemos defendido siempre nosotros no necesitamos mirar el horóscopo para saber sí tenemos que votar una cosa sí tenemos que votar otra como hacen otros grupos parlamentarios

que no se ha movido ni un milímetro de lo que defendió el pasado doce

que hemos demostrado que tenemos palabra a través de esa firma y creo que no lo podrá negar en fin

que en todo esto hace falta un proceso serio en la que participen los agentes sociales claro por eso nosotros venimos reclamando no hoy sino también desde el pasado doce de abril la celebración de un proceso participativo durante la tramitación también del

nosotros somos partidarios de que los vecinos participen ya han participado anteriormente si tienen que volver a participar que participen todas las veces que hagan falta eso yo creo que evidentemente se puede dar mayor pluralidad mayor seriedad

por eso lo defendemos por eso estaba en el acuerdo del doce de abril y por eso está en el acuerdo hemos firmado y que hoy vamos a aprobar es lógico evidentemente que de lo primero que se aprobó de lo primero que se puso en marcha

se puede estar proyectando que haya habido cambios también ha habido cambios en otros proyectos como por ejemplo la llegada del tren de alta velocidad a bilbao hay que adecuarse hay que adaptarse y yo entiendo que es mucho mejor

a las realidades que van surgiendo yo creo que una vez aclaradas todas esas incógnitas estamos en un momento perfectamente adecuado para que el proyecto constructivo que se redacte

que se van a construir en bilbao yo como decía voy a defender lo que defiende mi grupo no voy a defender lo que defienden otros cada cual verá cómo se posiciona y que

yo creo que si bien es lícito cambiar de posición creo que no es muy serio intentar cambiar el voto cambiar un posicionamiento echando piedras a otros grupos y quizás dentro de esa coherencia cada cual tiene que defender

han cambiado ese posicionamiento el por qué hoy no van a defender la ratificación de un acuerdo que firmaron que aprobaron que votaron a favor el pasado doce de abril y a mí qué quieren que les diga hoy me hubiera gustado que algunos hubieran ratificado lo que se aprobó

que hubieran dicho alto y claro que apuestan por esta línea cuatro de bilbao como una prioridad dentro de la extensión del transporte metropolitano de bilbao y sobre todo
me hubiera gustado que algunos hubieran aclarado si su prioridad verdaderamente es esta línea cuatro o antepone otras líneas frente a esta eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

hablar de metro bilbao parecería que fue ella y su grupo quien en la década de los ochenta impulsó su construcción pero como bien saben no fue asím porque esta fue

una apuesta claramente decidida al partido nacionalista y del partido socialista

y le he dicho también en la tramitación presupuestaria del dos mil quince que no

su grupo votó en contra de una enmienda transada entre nacionalistas y socialistas de un millón setecientos cuarenta y tres mil euros para el proyecto constructivo de

en cambio el pasado año sí que en el trámite de enmiendas a pactar con el gobierno para abstención y permitir la aprobación de los presupuestos

nada que ver con otras de sus enmiendas pactadas

no los van a trabar pues ya le digo deben ser cuestión de prioridades y de coherencia también

el principio de responsabilidad hace que analizar todas las variables la rentabilidad económica y también

la primera prioridad es mantener los servicios sociales mantener educación sanidad y prestaciones sociales y después la reactivación económica usted parece mentira que

pues se permita el lujo de vender humo como se decía antes por aquí habla de publirreportaje le gusta mucho utilizar la palabra publirreportaje

lo que hay para poder elegir cuál es la mejor solución para rekalde irala los barrios del sur incluido basurto

es muy clara dice que se haga el estudio informativo de la línea cuatro ampliando su alcance al sur de bilbao por lo tanto no estamos diciendo que no se haga la línea cuatro ni mucho menos ni mucho menos y bueno le llamaba el tren chu chu a lo que ahora es la línea tres puede venir a recordárselo los vecinos de otxarkuaga que era un tren chu chu respecto

cuestiones que se han planteado por el representante del partido socialista de contradicciones y creo que ha leído algún

la verdad es que yo no quería entrar en ese debate pero prometer que se ha dicho prometer en el dos mil doce que se van a iniciar las obras y que estarán finalizadas en el dos mil dieciséis saliendo del gobierno sin tener terminada la línea tres y teniendo conocimiento de la situación económica que se haya multiplicado por diez en tres años no sé si por la inercia que decía el señor alonso

la adjudicación de un tranvía que hoy estaría en funcionamiento y prestando

los vecinos de rekalde irala y demás pues yo creo que también todos tenemos que mirarnos esas contradicciones respecto al señor martínez de podemos

bueno pues también vamos a hablar de su programa electoral porque aquí vienen de salvadores vienen de salvadores de la injusticia social de

totalidad y lo que sí dice su programa electoral que es muy interesante que yo creo que es un programa electoral de dos mil dieciséis es decir que ya conocían toda la historia todas las injusticias sociales todas las carencias que tenían

solo nueve se referían a movilidad sostenible e infraestructuras y ninguna de ellas al metro

y es muy interesante lo que decían dice un sistema de movilidad dígaselo a los vecinos de rekalde

no motorizado todas las demás propuestas y especificaban electrificación de transporte público

metro bicicleta y tranvía son complementarias a esta idea central

en sus propuestas el metro es para decir no al de donostia por lo tanto por lo tanto coherencia

e infraestructuras no venga aquí poniéndose la chapa de que ustedes son los salvadores de rekalde y me llama la atención

su visión estrecha desde mi punto de vista y se lo dijo también a la consejera

la llegada del tren de alta velocidad a abando que por cierto aquí se ha dicho sí se sabía que iba a llegar pero no se sabía cuándo y cómo hasta el día veinticuatro de octubre de este año

ante un escenario en que la estación de abando va a ser el centro intermodal e interoperativo de bilbao y probablemente de bizkaia para todos los transportes a la margen izquierda

al exterior por tanto es muy importante tener en cuenta

quizás con el paso del tiempo y estas nuevas situaciones para los que viven inmóviles pues quizás vean como oportunidad esta nueva situación y el centro de referencia igual ha pasado o puede pasar de ser moyua

que moyua nosotros décimos que se estudien todas las alternativas y que se vea cuál es la mejor solución porque nosotros entendemos que

como están actuando para dar satisfacción a las necesidades de movilidad de los vecinos y vecinas de rekalde irala y del resto de barrios de la zona sur de bilbao como decía buscando la mejor solución posible para estos barrios y en definitiva para bilbao

y señor andueza pues sí me ha respondido lo que yo quería con su firma ya está y se reconoce y me alegro de la respuesta

siendo coherentes y que en otros temas también la firma que estampan en algunas otras

que sean coherentes con lo que dicen en la calle y con lo que dicen en su programa en esta

medalla para usted por estampar la firma a aquí yo no tengo ningún problema en firmar ni con usted ni con la señora llanos ni con nadie ni apoyar

esta transacción porque es lo que ya aprobamos en abril es ser coherente y creo que

ser novedad este tema y

prisa prisa diez años

prisa desde cuándo me alegra

el programa electoral no somos nuevos pero también vamos aprendiendo y sobre todo una cosa que no podemos ni elkarrekin podemos sino la trayectoria que tenemos que suele ser nuevo tenéis el programa de dos mil dieciséis no no hay una trayectoria y yo con los vecinos y vecinas yo me he sentado y yo decía

visto las nuevas propuestas que hay los estudios que salen los proyectos que salen

a lo largo de los años hemos modificado nuestra postura la que

bien reflejado pero desde abril cambiar la postura qué ha cambiado desde abril una cosa es del año noventa y seis tenía yo nueve años además

pero desde abril cambiar la postura desde abril

por una playa de vías así de grande en bilbao y que iba a llegar a abando no se sabía

decía usted que yo vivía vivía en frente de la calle ezkurtze delante de una playa de vías que ha estado años y años sin hacerse curiosamente a la del centro de bilbao se tapó enterito y

esas vías por un problema entre el ayuntamiento el gobierno y el gobierno vasco se ha hecho pero cuánto se ha tardado en tapar esas vías yo lo conocía perfectamente las mercancías que pasan o que pasaban por allí

de margen izquierda también sabrá lo que está en los planes territoriales sobre los posibles futuros de las cercanías de margen izquierda

de sus planes no de los míos yo creo que todo eso se sabe todo eso hay que cambiarlo de abril a aquí pues

chapas ninguna con seriedad lo que se

estamos casi acabando el año pues que se haga que se cumple tampoco estamos pidiendo tanto no estamos pidiendo nada más que lo que se aprobó por unanimidad en este parlamento se lleve

adelante y si habría otras soluciones a mí me da igual que a mí me engañan pero no engañen a los vecinos y vecinas de rekalde de irala de peñascal etcétera no engañen a mí me da igual a mí personalmente me da igual

con este tema si lo que en abril valía pues ahora también vale porque no hay nada nuevo es que no hay nada nuevo si hemos descubierto una falla en no sé donde tienes que cambiar todo el proyecto vale

pero la transferencia de las vías de feve una línea de cercanías y el tren de alta velocidad que va a llegar a abando

habremos visto reportajes en periódicos durante quince años domingo tras domingo que va a llegar y cómo va a ser la estación y tal y va cambiando y tal pero y eso qué afecta a la línea del metro

hagan escusas baratas para algo que es cambiar radicalmente lo que se aprobó lo que se aprobó en abril lo vuelvo a decir estudio del proyecto constructivo dos mil diecinueve y

señora llanos siempre llama populistas a aquellos que están a la izquierda no lo son ciertamente lo son pero usted no se queda corta no se queda corta

un cero en matemáticas en primer lugar porque usted ha dicho que no se va a aprobar vuestra enmienda transaccional y se va a aprobar gracias a nuestra abstención orduan

bai bai se va a aprobar sí sí bueno

habéis interpuesto una propuesta de interpelación para declarar líneas prioritarias a la ele cuatro y a la ele cinco y además apoyáis la supersur

sobre la coherencia señor andueza mesedez gobernu batean zaudete